ekitateaz ari naiz la equidad es una de las principales características del sistema educativo vasco a lo largo de los años la sociedad vasca se ha otorgado un sistema educativo inclusivo y plural

para que niños y niñas puedas formarse en ese sentido

un importante sistema de ayudas que abarca las distintas etapas educativas desde las becas y ayudas al estudio para la escolarización de estudiantes de niveles no universitarios a las becas para realizar estudios universitarios u otros estudios superiores ese completo sistema de ayudas

las becas que anualmente concede el gobierno vasco han favorecido a miles de familias pero tan importante como la percepción en sí son la información ofrecida a las familias

los plazos en los que se abona y otros aspectos siendo eso así el grupo parlamentario euzko abertzaleak traslada a la consejera de educación la siguiente pregunta qué mejoras ha llevado a cabo el departamento de educación en el sistema de becas no universitarias

en relación a la tramitación de las becas aunque todavía quedan algunas solicitudes por resolver este curso hemos aprobado ya un total de ciento ochenta y nueve mil becas destinadas a ciento veintisiete mil quince

hablamos por tanto de un importante volumen de solicitudes de ayuda que hemos querido agilizar en beneficio de las familias y también de los centros educativos

desde el departamento de educación hemos remitido las solicitudes de becas ya cumplimentadas a todas las familias que lo solicitaron el curso anterior en total hemos enviado

ya cumplimentadas las familias tan solo han tenido que validar dicha documentación bien electrónicamente o en el centro educativo

agilizar el posterior análisis y concesión de las ayudas económicas este era otro de los objetivos que perseguíamos y lo hemos conseguido hasta ahora

el curso pasado conseguimos resolver el veintisiete coma siete por ciento de las solicitudes

y este año hemos elevado ese porcentaje hasta casi el ochenta por ciento esto es la mayoría de las familias ya recibieron su ayuda económica antes de finalizar el año

tenemos por tanto garantizada la universalidad en la enseñanza y seguimos comprometidos también con los servicios complementarios como transporte y comedores escolares sin duda

cincuenta y ocho mil quinientos becas de comedor destinando para ello casi treinta y siete millónes de euros o tres mil trescientos becas de desplazamiento y seguimos trabajando en ese sentido

la posibilidad de modificar las becas para material didáctico para que dicha ayuda se destine directamente a los centros educativos

una mayor autonomía de centro una vez finalizado dicho análisis lo presentaremos en la comisión de educación eskerrik asko eskerrik asko uriarte

que se asienta geográficamente en siete territorios constituye un sujeto jurídico y político con derecho y capacidad para decidir sobre su futuro a ser consultado

proclama que el pueblo vasco tiene derecho a la autodeterminación

la alarma generada trata de matizarse así mismo pero sin apearse de la idea principal

además de perversión ha dicho usted que le parece una distorsión de la realidad

vuelve a concepciones de la política de tiempos pasados

justo a las puertas de una de las mayores movilizaciones que se va a producir este país

junio de mano de gure esku dago menosprecia al lehendakari etxegaray afirma que su cometido es que se respete la constitución española y podría seguir así porque usted no ha dejado

euskal herria bildu tratará por todos los medios de poner límite a esta deriva de su gobierno que trata de vaciar de contenido el derecho que tiene el pueblo vasco a decidir su futuro

del principio democrático utilizado por concepto derecho a decidir lo perverso mire conformamos una sociedad plural en un entorno también plural

toda codecisión comporta reconocimiento responsabilidad y exigencia recíproca codecidir es acordar las condiciones

y los límites hacerlo como resultado de un procedimiento legal y pactado hablamos de un derecho pero quizás deberíamos hablar más

quizás deberíamos hablar más de un principio que no de un derecho y además debemos primar la obligación que nos corresponde y hemos asumido en este parlamento

actualizar el autogobierno sumando el principio democrático y el principio de legalidad acordar los contenidos y su normativización jurídica nuestra obligación es sumar entendiendo que el respeto a la legalidad no debe vulnerar el principio democrático que supone atender y respetar la decisión de la ciudadanía vasca

que solo los incoscientes o un resentido puede criticar el acuerdo sobre las pensiones alcanzado entre el partido nacionalista vasco y el pp

es complicado lehendakari tiene que elegir desautorizar a su consejero de economía y pedir perdón a los pensionistas de este país o hacer suyo el insulto del señor azpiazu a las sesenta y cinco mil personas que salimos este fin de semana en euskadi

en relación a la cuestión de las pensiones todo el gobierno incluido el consejero

hacemos nuestro el acuerdo alcanzado en esta cámara el día uno de marzo con un amplio consenso le leo un punto fundamental aprobado por usted y su grupo

usted critica ahora el preacuerdo alcanzado para vincular las pensiones en el ipc por insuficiente este tipo de actitudes oportunistas
son las que criticó el señor azpiazu quien en absoluto hizo referencia a las personas pensionistas eskerrik asko eskerrik asko

lehendakari jauna en su intervención yo entiendo que nos acaba de llamar oportunistas y que lo de incoscientes y resentidos iba más bien por nosotros o por otros grupos que hayan criticado el acuerdo

estas descalificaciones por defender los derechos de cientos y miles de pensionistas de este país es más prefiero que el destinatario

a las calles de este país a criticar y denunciar los pactos de su partido con el pp y sabe el motivo que

nos importa mucho más lo que sienta la ciudadanía vasca que las descalificaciones que salgan de la boca de este gobierno y se lo hemos dicho ya unas cuantas veces y aquí creo que toca repetirlo su gobierno tiene auténtica a la crítica viven en una torre de marfil que no toca la calle más que

y lo peor es que este lehendakari al final se ha acabado creyendo este personaje

de margaret thatcher y esa alergia a la crítica y la posición

ese tipo de insultos del señor azpiazu ya sea a los pensionistas ya sea a nosotras pero especialmente a los colectivos de pensionistas

y el paternalismo con el que se dirigía y se dirige su gobierno ayer mismo pudimos escuchar también al director de lanbide a la mayoría de la ciudadanía vasca cuando

la imposibilidad de unas pensiones dignas de

han querido colgarse la medalla de salvadores de pensiones con este parche de última hora porque al final lo que es es un parche y

dígale usted a las viudas a las personas que cobran pensiones no contributivas que están con las mínimas que eso

al acuerdo con el partido popular es de resentidos cuando la subida de

de estos meses atrás dígaselo cuando ya has conocido que el pp

y en el de dos mil dieciocho ya les está rebajando las miajas que rascaron el veinticinco de abril en ese acuerdo al que usted alude ya se sabe

ya veremos esos parches nunca van a callar a nuestros mayores y a nuestras pensionistas estos pactos son un dolor añadido

que de verdad le importan nuestros pensionistas tiene dos medidas al alcance de la mano

y el veintiséis de mayo acérquese con humildad a la manifestación que va a haber en las calles de euskadi

señor martínez está bien tirar permanentemente de tópicos fíjese si yo tuviera

mire no considero coherente ni responsable criticar un acuerdo quince días después de haberlo reclamado en esta cámara y esto es lo que hacen ustedes

le recuerdo que el preacuerdo en esta materia entre el partido nacionalista vasco y el gobierno español se alcanza

y que su partido tiene setenta y uno no entiendo a qué están esperando para poner a trabajar esos setenta y uno votos y conseguir lo que dicen que pretenden señor martínez

mire le recuerdo que donde ustedes gobiernan no tienen competencia en materia de pensiones como tampoco la tiene el gobierno vasco señor martínez

y hemos puesto en marcha un sistema para complementar la renta de las pensiones de las personas pensionistas que más lo necesitan algo que ustedes podrían hacer pero no lo hacen

eta lortzea ere mire le aseguro que tendría algo más de credibilidad

me da la impresión de que lo que tratan de hacer es utilizar a las y a los pensionistas por un interés partidista

la competencia de las pensiones le repito es del gobierno español y yo soy consciente de las dificultades de las personas con pensiones más bajas y aquí

que la renta de garantía de ingresos sustituya las carencias del sistema público de pensiones que corresponde y es responsabilidad del gobierno español y solo

serio y responsable y cumpliremos los compromisos recogidos en nuestro programa vamos a seguir reclamando la transferencia del régimen económico de la seguridad social como recoge el estatuto incumplido y que también está en nuestro programa de gobierno nuestra obligación es

una respuesta a sus demandas desde el principio de realidad y sostenibilidad señor martínez como corresponde a una sociedad

guztioi el departamento de medio ambiente planificación territorial y vivienda comenzó su andadura

inicialmente la única ley contemplada era la del desarrollo del proyecto de ley general de medio ambiente cambio climático y conservación de la naturaleza que siendo proyecto iba a asumir competencias acciones compromisos y actualizaciones todo en un único texto normativo señor consejero

se ha reclamado en este mismo parlamento en esta misma cámara la necesidad de revisar y actualizar las leyes que afectan al ámbito medio ambiental europa marca las líneas estratégicas aprueba directivas y condiciona las leyes de los estados miembros y en consecuencia y en el caso de españa condiciona también a los a las comunidades autónomas por tanto a euskadi el ámbito de aplicación de la ley inicialmente contemplada por el gobierno vasco iba a ser tan extenso como complicado

debe de ser una herramienta útil y fuerte que permita actuar la ley de conservación de la naturaleza tiene que ver con diferentes administraciones

y la del cambio climático va a exigir debate político y social para lograr establecer importantes compromisos a cumplir en la transición ecológica de euskadi

en vez de uno tal y como se había recogido en el calendario legislativo que conocimos a inicios de la presente legislatura

que esta decisión responde a un análisis jurídico y se habrá tenido en cuenta la factibilidad de la tramitación legislativa y parlamentaria por todo esto señor consejero

la presente pregunta cuál es la fase de elaboración en la que se encuentran estos tres proyectos de ley eskerrik asko eskerrik asko andueza jauna erantzuteko arriola jauna zurea da hitza

gracias señora presidenta señor andueza usted ha dicho efectivamente

se había contemplado como un único proyecto de ley pero puedo asegurarle que es una decisión bien fundamentada sabe usted que en líneas generales las administraciones operan el principio de continuidad

de que en medio ambiente y cambio climático y conservación de la naturaleza que se concebía como usted bien ha dicho

actualizar y ordenar toda la legislación anterior sobre esta amplia materia un campo además sometido a importantes cambios

promovida desde la unión europea pero al retomar los trabajos previos

llegamos a dos conclusiones la primera que concentrar toda esta temática

texto extensísimo de compleja tramitación parlamentaria y todavía más compleja aplicación y la segunda

de esta posible ley marco unos destinatarios específicos claramente diferenciados tenía todo el sentido

en este sentido la protección del medio ambiente impacta de lleno

a los ayuntamientos la conservación de la naturaleza tiene como sujetos singulares por una parte ayuntamientos y diputaciones pero también al sector primario

y el cambio climático es una materia muy transversal que involucra a departamentos y sectores de todo tipo

todos ellos en la fijación de objetivos y compromisos para

de nuestro modelo de vida estas son las razones por las que hemos decidido acometer la elaboración de tres normas diferenciadas la ley de administración ambiental

buscando una mayor simplificación y agilidad sin merma al rigor la ley de conservación del patrimonio natural que incorporará aspectos de cambio climático

conservación del patrimonio natural vasco establecerá la clasificación de espacios protegidos

y resaltará entre otras cuestiones el valor de los espacios periféricos y los corredores de transición ecológica y por último la ley de cambio climático

y que a pesar del consenso general que obtuvo no fue aprobada que irá en la línea de la estrategia

y esperamos tramitar en breve plazo la orden de aprobación previa de los proyectos de ley de administración ambiental y de conservación del patrimonio natural dando inicio al proceso de consulta y participación pública de todos los gestores implicados y de la propia ciudadanía

es que las tres leyes pudieran ser aprobadas por el consejo de gobierno y remitidas a esta cámara en el primer cuatrimestre del próximo año dos mil diecinueve

muchas gracias señora presidenta buenos días señor lehendakari consejeros señorías hoy hace

tenemos estabilidad estamos en plena fase de recuperación económica y social tiene usted un gobierno de coalición

contribuyendo a que haya ese clima de estabilidad pero ya sabéis yo soy de vitoria vitoria los días de verano cuando hace bueno pues por la tarde sale el norte y a veces terminan en tormenta y ese buen día

es el derecho de autodeterminación de toda la vida yo le he escuchado atentamente en la formulación que ha hecho aquí esta mañana y cuando nos explicaba que ese derecho que ustedes llaman a decidir es una expresión de un principio democrático que usted ve que puede oponerse a un principio de legalidad quiero aclarar ese asunto

que la mayoría puede estar en democracia por encima de la ley pero la mayoría no puede estar por encima de la ley la gracia de la democracia y la clave es que la mayoría se sujeta a las leyes y que las leyes solo se pueden modificar de acuerdo con la propia previsión legal

entonces arrogar a esa mayoría el derecho de imponerse sobre las leyes porque la ley

de la democracia y yo creo que por tanto partimos de un error de base y un error de concepto que es lo que lleva a estar formulación del derecho a decidir o derecho de autodeterminación

con aquella parte de la cámara todo esto lo hemos visto señor lehendakari con preocupación en una expresión política que tiene pretensiones de transformarse en norma jurídica en la ponencia de autogobierno donde efectivamente si una propuesta profundamente soberanista se define

el pueblo vasco pueblo vasco que incluye siete territorios unos en españa otros en francia en distintas comunidades autónomas y que sería el titular

sino su característica principal es que tenemos una identidad y una identidad que necesariamente

nacionalista eso va en contra de cualquier principio democrático básico que defienda que la comunidad política nos convierte en ciudadanos con derechos y nos permite tener identidades complejas y que por tanto ampara sociedades plurales y a mí me preocupa que esa sea

derecho a decidir que por tanto se predica del pueblo vasco que se sustrae a la decisión del conjunto de los españoles en lo que les afecta en el ámbito constitucional

porque siendo así que el sujeto político son esos siete territorios aquí se decide solamente entre tres no sabemos tampoco cómo se

derecho a decidir sabemos que la formulación práctica de ese derecho conduce directamente

bildu les sigue y esa es una mayoría parece una mayoría fácil les siguen en eso en ese camino de ruptura

supongo que es más compleja pero da frutos mucho más positivos para el conjunto de la sociedad vasca usted tiene una responsabilidad y yo le pido que enfríe ese debate que retire esa propuesta que hable con su grupo parlamentario que entiendan que eso no puede ser legal y que tampoco nos lleva a ningún camino de consenso y si me permite que se lo diga de verdad y sabe que se lo digo desde el afecto que reflexione porque tanto empeño en el derecho a decidir al final puede tener la consecuencia de que pierdan ustedes

me pregunta usted por qué significa para mí el derecho a decidir y le contesto el derecho a decidir es un principio democrático básico ejercer el derecho a decidir es consultar a la ciudadanía y en nuestro caso y en lo que respecta a las relaciones con el estado por ejemplo decidir de manera legal y pactada

cuando ha hecho usted una incursión en una distinción entre democracia y ley hombre yo creo señor alonso y le digo con todo el afecto también que la democracia y la ley tienen que ir de la mano y al unísono

por qué no es posible cambiar la ley si la mayoría es democrática bien entiendo que es necesario normativizar jurídicamente el principio democrático

y en las sociedades democráticas occidentales este principio no es un elemento de confrontación sino un punto de encuentro que es tal y como lo planteamos nosotros yo le pediría que deje de ser agorero de un apocalipsis que no se cree ni usted mismo señor alonso

y constructiva a avanzar en un acuerdo que sea ratificado por la sociedad vasca habla usted del verano y de los nubarrones y de las tormentas estamos en primavera afrontemos desde el concepto de estar en primavera mire el objetivo de la ponencia parlamentaria a la que usted alude es

y tenemos la oportunidad de lograrlo si trabajamos con auténtica voluntad de acuerdo respetando el pluralismo político y asumiendo los diferentes sentimientos de pertenencia nacional que se dan cita

el presente y el futuro de nuestro autogobierno y es aquí donde corresponde normativizar el principio democrático establecer en qué condiciones con qué mayorías

y acordado reclamamos la capacidad de convocar consultas de manera legal y pactada se trata de aplicar el mismo procedimiento que se utilizó en mil novecientos setenta y nueve con el estatuto de autonomía pedimos que se nos reconozca la facultad de consultar a la sociedad vasca incluso para conocer también la posición de la ciudanía sobre un nuevo marco de relación con el estado se me

lo que en programa electoral pudiéramos plantear mire le digo claramente lo que planteamos el respeto a la voluntad popular debe encontrar en cada momento un cauce de aplicación y su entronque en el ordenamiento jurídico señor alonso el principio democrático exige dotar de un valor relevante y primario a la decisión de la ciudadanía vasca lo que requiere que el estado asuma la obligación de negociar y acordar los ajustes constitucionales

precisos para responder al deseo expresado por la ciudadanía vasca excluyendo el propio estado en suma el principio de unilateralidad que impone

dicho lo cual yo señor alonso y volviendo otra vez a lo que es el objetivo de la ponencia parlamentaria y a lo que es la situación en la que estamos yo le reitero un ofrecimiento

aprobado bajo el principio legal y democrático sea cumplido en su integridad demuestre el respeto que proclama una decisión acordada pactada con el estado y ratificada cumplir lo pactado y legalmente refrendado no debería ser una opción

tenemos la oportunidad de plantear una propuesta viable política legal y jurídicamente una propuesta que tenga recorrido institucional y sea ratificada al fin y al cabo

la sociedad tiene ese derecho nuestra obligación es tratar de alcanzar un acuerdo institucional que pueda ser refrendado por la sociedad vasca eskerrik asko eskerrik asko

ha retirado la acusación contra los imputados en contra del criterio de la fiscalía

cree que es edificante para la ciudadanía vasca que el gobierno vasco no exija responsabilidades a los imputados por corrupción eskerrik asko

egun on guztioi permítame señora macazaga hacer una precisión a su pregunta una precisión que me parece que es fundamental en este caso el gobierno vasco

la causa a la que usted se refiere está vista para sentencia y el gobierno vasco se ha mantenido hasta el último segundo en el juicio oral haciendo sus alegaciones

que toda persona deba responder de lo que resulte de un juicio justo tramitado con arreglo a las garantías oportunas

dan contratos a dedo y por la puerta de atrás a empresas de su propiedad y con sobreprecios señor margüello

alto cargo con inclán niegan irregularidades de hecho el señor inclán

por la prensa como suele hacer el partido popular con los casos de corrupción

sí afirmó y lo hizo en el propio juicio que se trataba de una trama sistemática para beneficiar al señor margüello y de hecho la fiscalía también cree que hubo corrupción hasta el señor elorriaga que es uno de los acusados que era una trama organizada y es que todos y todas vemos corrupción todos menos su gobierno señor erkoreka qué casualidad no sé si tendrá algo que ver con el hecho de que según se ha publicado el señor margüello inclán y darpón y compañía son amiguísimos o quizás

la cuestión es que si por su gobierno fuera señor erkoreka estos presuntos corruptos se irían de rositas

que hayan estado haciendo cosas tan feas como malversación prevaricación fraude o negociaciones de actividades prohibidas a funcionarios públicos

pero acto seguido y por detrás su gobierno se pone al servicio de su partido el pnv y de personas acusadas por corrupción

de todos y todas las vascas siete millónes de euros que nos robó esta gente a la ciudadanía vasca hoy su gobierno no tiene la decencia

y la verdad es que este trato de favor de su gobierno no solo es políticamente insostenible sino que además es reprochable éticamente

puede mirar usted a la ciudadanía vasca y decirle que tiene que cumplir con sus obligaciones cuando su gobierno permite dejar impune a personas que como ellas mismas reconocen han cometido delitos ustedes les quieren dejar libres de culpa y no señor erkoreka no confundimos el papel de la acusación y el papel del juez

y hoy el principal interesado el principal afectado el gobierno vasco no acusa y no denuncia

y fácil a los delincuentes vinculados a su partido pero sobre todo señor erkoreka después de que su gobierno haya tomado la indecente decisión de no pedir penas para los acusados del caso margüello

asumirán ustedes públicamente alguna responsabilidad mila

creí que me fuera a hacer semejante honor segundo mire yo le puedo asegurar que no tengo personalmente ninguna relación con ninguno de los acusados absolutamente ninguna ni de

a ninguno por tanto poca relación o poca influencia puedo tener desde ese punto de vista

reconocerlo en los que la demagogia

la búsqueda de expresiones altisonantes no sirven para nada lo que vale es la seriedad el rigor y la garantía y aquí

el gobierno vasco está actuando con arreglo a lo establecido por los servicios jurídicos del gobierno

el criterio de los servicios jurídicos del gobierno lo conoce la cámara porque lo remití yo en un dossier de ciento veintisiete folios cuando se produjo el auto de apertura del juicio hace ya más de un año obran en la cámara ciento veintisiete folios

que los servicios jurídicos de la cámara ya decían allá que no se trata de un asunto sencillo sobre todo por dos motivos por dos razones la razón primera mire este es un asunto en el que se han producido ya siete pronunciamientos judiciales dos del orden jurisdiccional penal

perdió el gobierno vasco las posiciones del gobierno vasco defendiendo determinadas posiciones no prevalecieron no prosperaron en ninguno de esos siete procedimientos segunda razón

de dos directores de la oficina de control económico del gobierno la máxima instancia de control económico del gobierno de dos gobiernos diferentes ideológicamente dispares que no tienen nada que ver entre sí pero sin embargo coincidieron en una cosa en constatar que no se había producido quebranto económico a la hacienda vasca de ningún tipo en ambos casos

que alguna coherencia tiene que producirse entre la declaración entre la posición de los dos máximos responsables de la oficina de control económico del gobierno

dice usted qué ocurrirá en el supuesto que se produzca una condena no tenga ninguna duda mire el gobierno se ha mantenido hasta el final del juicio oral

que tiene configurada desde el principio del juicio oral manteniendo sus posiciones como actor civil y fijando su posición

mire todos los expedientes eso sí si el juez considera o si la sentencia considera en este caso

el gobierno vasco actuará hasta recuperar el último céntimo de euro del que se acredite el procedimiento que fue ilegalmente utilizado que fue utilizado con fondos

no se preocupe será contundente y clara la actuación del gobierno en este sentido pero con rigor con seriedad sin demagogias eskerrik asko erkoreka jauna

entzuten ditut eta horregatik sentiberatasuna bai edo ez entzuten ditut gobernuaren erantzunak el gobierno insiste en que no va a mover ficha

víctimas y zoido lo decía en el pacto antiterrorista dos caras de una misma moneda del mismo mensaje escucho también a sus socios de gobierno que participaron ayer en la reunión del pacto antiterrorista y por boca de

y esto me preocupa y en cierta manera también veo cierta contradicción porque

decía que no ve una actitud de cambio en el gobierno español en una entrevista de hace unos pocos días decía que más allá de alguna declaración de algún

rápidamente desautorizada por cierto no percibe tal voluntad

si es esa la sensación que usted tiene precisamente porque han demostrado el gobierno español ha demostrado que en este ámbito no tiene palabra desde la oferta de paz por presos de aznar hasta las declaraciones del señor sémper

horas agotado para traer el alejamiento

al fin de la dispersión han demostrado que no tienen palabra y me sorprende que usted en cierta manera le otorgue esa credibilidad al señor

actitud de reclamación de exigencia hacia rajoy como le digo para hacer palanca y para que el estado se mueva y ven en usted una actitud más reivindicativa en ese ámbito señor lehendakari porque tenemos urgencias tenemos urgencias humanitarias

y tenemos urgencias desde un nuevo tiempo desde el principio de realidad porque debemos de transitar de una política excepcional a una política ordinaria y ojalá

y en eso estamos y en eso tiene compromiso eh bildu y tiene voluntad de atender a esas urgencias y ojalá más allá de intencionalidades o de voluntarismos que vea en su interlocutor usted vea un impulso

espainiako gobernuaren presidenteari propuesta de acuerdo para compartir una reorientación de la política penitenciaria

lehen aipatu dudana criterio para una nueva reubicación

lanean ildo honetan y desde un punto de vista ético y con todo el respeto a la memoria de las víctimas se me hace incomprensible que se haga del

una condición política esta medida solo provoca sufrimiento a las familias personas que no han cometido ningún delito y hacer sufrir innecesariamente no es hacer política no es un comportamiento ético y tampoco es legal según la legislación penitenciaria

behin ere pentsio duinak eskatzeko el acuerdo alcanzado en madrid

es puntual y no soluciona los problemas estructurales de las pensiones y desde luego no ha conseguido desactivar las calles

esta cuestión no es nueva en esta cámara ya que se han planteado múltiples iniciativas en relación al sistema público de pensiones sin ir más lejos hoy tres

al gobierno central a las cortes generales y al pacto de toledo el parlamento vasco ya se pronunció en este sentido el uno de marzo con amplio consenso político respecto a esta cuestión

que no necesita que le recuerde los puntos de acuerdo estamos comprometidos con las personas que perciben pensiones bajas que no le quepa la más mínima duda que no le quepa duda el gobierno vasco es muy consciente de las difíciles situaciones que se dan

ari gara beraz garantizamos la renta de garantía para las personas pensionistas cuyos ingresos no alcanzan el mínimo establecido ofrecemos la prestación complementaria de vivienda

del copago farmacéutico huyamos de debates partidistas cuando se trata de consolidar y garantizar

como es el sistema público de pensiones actuemos con

planteemos soluciones para las personas pensionistas de hoy y medidas para que se garanticen las pensiones de mañana eskerrik asko

el tema de huir de debates partidistas resulta bastante complicado cuando un partido político pone encima de la mesa

unos presupuestos señor azpiazu y de todas formas estamos hablando de acuerdos de responsabilidad de eso venimos hablando los últimos meses cuando hemos traído en esta cámara como usted decía muy bien en numerosas ocasiones el debate sobre las pensiones dignas y sobre los mil ochenta euros eta egia da

y desde ese principio de realidad desde el principio de realidad que viven las pensionistas y pensionistas en esta comunidad autónoma

condenadas muchas de las mujeres que cobran pensiones consideramos que sí es posible que sí es posible esa pensión

y el acuerdo alcanzado entre el pnv y el pp en madrid lo demuestra en ese acuerdo el pnv no ha dicho de dónde va a salir el dinero para ese incremento no se ha dicho quién lo va a pagar

hay herramientas suficientes para hacer efectivos esos acuerdos y apelando a esa función a la que hacía mención el lehendakari en su primera intervención sobre las pensiones de esos acuerdos a los que tenemos que alcanzar en esta cámara nosotros lo que planteamos es esta cuestión de las pensiones mínimas es una cuestión de llegar a acuerdos de esas actuaciones responsables es una cuestión de poner

y decidir cuándo y cómo afrontamos este camino hacia la dignidad de las pensiones
ese es el camino cuando hay voluntad política lo decía también arantxa tapia hay posibilidades eskerrik asko kortajarena andrea amaitu zaizu denbora azpiazu jauna zurea da hitza

ni el foro adecuado para debatir estas cuestiones pero que también hay que tener claro cuál es el objeto de la renta de garantía de ingresos bere helburua ez da ezinezkoa izan litzatekeelako

llevan tres años gobernando o cogobernando en municipios y comunidades que también ha habido movilizaciones

en estos ámbitos en navarra por ejemplo no se garantiza esa cuantía

ninguna ninguna y hay que dar la vuelta también a la ecuación es decir cómo pretende financiar

de dónde van a sacar el dinero de qué nuevos ingresos y de qué partidas van a quitar

y demagogia barata utilizar a nuestros mayores es jugar con la expectativa de las personas confundirles

político debemos hablar con responsabilidad y no crear falsas esperanzas porque en definitiva

requiere un debate independiente e integral que exige un amplio consenso político y amplitud de miras porque todos y todas vamos a ser pensionistas

gauzak okertzeko le preguntaría señor erkoreka qué está pasando en el eustat qué está pasando en el eustat para incumplir el acuerdo parlamentario de dos mil dieciséis qué está pasando en el eustat para que exista una conflictividad tan elevada que ha llevado a que hoy

la grada y la calle qué está pasando para que ustedes hayan provocado con su actuación la unidad sindical que no es posible en otros ámbitos qué están haciendo ustedes para no atender unas peticiones unánimes que se resumen en los cinco acuerdos

el primero que se hiciera un estudio en el eustat para ver cuántos trabajadores hacían falta para desarrollar la actividad normal y habitual del eustat el segundo cómo organizar la actividad del eustat para que todos los trabajadores que están en plantilla puedan trabajar durante toda la jornada el tercero

la relación de puestos de trabajo del eustat a través de una medición de las cargas de trabajo de todos los puestos y el cuarto establecer afincar consolidar los puestos de trabajo a través de una oferta pública

llegado con los diferentes sindicatos a lo largo de todo este tiempo

y de quienes están ostentando responsabilidades en la viceconsejería de función pública ahí están las responsabilidades y la pregunta es qué les han hecho estas trabajadoras para que las traten así qué les han hecho estas cien personas ochenta por ciento de mujeres

y que algunas llevan veintisiete años de antigüedad en la empresa qué les han hecho estas encuestadoras estas inspectoras para que las tengan a día de hoy en unas condiciones precarias como yo creía que no podía haber desde que estuve con el tema de sos deiak es acaso que consiguieron en dos mil diez

que les hacía trabajadoras fijas después de que hubieran estado con contratos encubiertos las condiciones de estas personas son cuando menos lamentables trabajan a tiempo parcial todas ellas como máximo trabajan entre tres y seis meses al año y por lo tanto

de tres a seis meses al año y eso va a tener una repercusión en su pensión y sin embargo tienen que tener disponibilidad plena para asumir todos los contratos y todas las campañas que se vayan a hacer y además tienen que desarrollar ese trabajo en cualquiera de los tres territorios son a día de hoy el paradigma de la precariedad hasta tal punto

en dos mil diez las sentencias que las hacían trabajadoras fijas cuando estaban contratadas digamos bajo cuerda en el eustat porque ya desarrollaban su trabajo

se les pagaba con cargo a la partida de los presupuestos que se denominaba

material fungible material fungible

son personas son personas con dignidad y derechos son trabajadoras públicas que se levantan todos los días para hacer su trabajo lo mejor posible y para sacar este país adelante y para que este país tenga las estadísticas que necesita no son material fungible señor erkoreka

le voy a pedir un favor no me reproche a mí no me restriegue afirmaciones y posiciones que yo jamás he defendido

que fueran material fungible yo respeto como personas tanto como usted a ese colectivo respeto su dignidad y su derecho a trabajar exactamente igual que usted

sus expresiones para provocarlos pero por favor no me reproche ni ese tipo de expresiones

por tanto vamos a ser rigurosos en primer lugar le pido por favor si quiere que rompamos el rigor tampoco tengo inconveniente tendré más dificultades que usted porque usted es parlamentario y se puede permitir alegrías que yo desde el gobierno no me

yo deslizarme por ese terreno bien dicho esto permítame dos observaciones previas a su interpelación primero usted me interpela

no de ley que se aprobó no en esta legislatura en la legislatura anterior hace dos años y pico como usted ha puesto de manifiesto una legislatura distinta con una cámara diferente con unas

que las proposiciones de ley decaen al término de la legislatura decaen dejan de surtir los efectos que puedan surgir no por tanto rescatarlos dos tres o veinte legislaturas después

pero desde luego del punto de vista de la acción política y de la acción de impulso de la labor de gobierno pues tiene una relevancia francamente secundaria segundo

se gestiona por lo menos siempre por dos departamentos uno el departamento sectorial responsable de la organización del servicio

genéricamente responsable de la elaboración de las rpt y de la ordenación general de los recursos públicos

labor interpeladora sino sencillamente porque hay planteamientos que usted formula que lógicamente yo como responsable de uno de los departamentos pues a lo mejor no puedo responder sencillamente cuestiones organizativas que no corresponden al ámbito responsabilidad que cae bajo mi departamento bien

vamos a centrarnos entonces en lo que estamos hablando estamos hablando de un organismo autónomo

al que la ley le ha recomendado la responsabilidad de elaborar oficialmente la estadística del gobierno como todos los institutos y organismos de esta naturaleza

desarrolla su labor sobre la base de unas encuestas

unas son anuales otras son bianuales quinquenales decenales y luego hay otras incluso que son coyunturales de periodicidad inferior a un año lógicamente las necesidades de personal para responder a esos requerimientos que son intermitentes que son irregulares en el tiempo

por eso la labor del eustat se desarrolla por parte de dos colectivos

funcionarios y funcionarias de empleados públicos que se ocupan del diseño ordenación y elaboración de los planes estadísticos propiamente dicho con su personal auxiliar que conforman aproximadamente una plantilla de ciento seis personas y después otras plantilla otro colectivo encargado de elaborar

elaborados en la conformación estadística bien los primeros le he dicho que son funcionarios los segundos los que conforman este segundo colectivo que hace la labor de campo

laborales temporales en el marco de lo que establece el artículo diecinueve de la ley de función pública

se inició un proceso de judicialización de la situación de este personal con recursos interpuestos ante la jurisdicción laboral

reconociendo su situación y reconociendo que efectivamente primero responden a una necesidad permanente del gobierno por lo tanto tienen que ser indefinidos y segundo

tienen que ser indefinidos lo dice las ciento uno sentencias que se dictaron en esta materia

pero discontinuos no es expresión mía es expresión de las propias sentencias indefinidos

pero continuo un caso de los noventa y nueve ahí las sentencias tienen claro las sentencias había que ejecutarlas pero antes de que

ya se produce una reunión entre la administración y la representación de ese personal de este colectivo

febrero del año dos mil once sobre el acuerdo se titula así acuerdo regulador de llamamiento de personal declarado indefinido discontinuo

esto lo firman todos los sindicatos menos uno que no es ela pero hay uno que se queda fuera bien y a partir de ahí se adquiere una serie de compromisos el primero de los cuales tiene que ver con la elaboración de un estudio organizativo que permita después poner las bases de la regularización

como todas las plantillas de la administración pública con su correspondiente rpt y con la incardinación y los mecanismos de funcionamiento ordinario de la función pública

se comienza la elaboración de la relación de puestos de trabajo hay una primera propuesta

y se presenta a la mesa sectorial es entonces cuando se registra la proposición no de ley

si entre medio hay actividad hay contactos hay reuniones hay negociaciones no se debate y vota hasta un año después pero se aprueba esa resolución a la que usted ha hecho referencia en febrero del años dos mil dieciséis que consta de cinco puntos

otra referencia también de los cinco puntos y le voy a decir que hasta donde es posible el gobierno ha dado

a esos puntos recogidos en la proposición no de ley del año dos mil dieciséis de otra legislatura insisto pero ojo en el marco de lo que la administración tenía acordado con la representación sindical de estos colectivos en el periodo dos mil diez dos mil doce

el quinto punto de esa resolución de esa pnl decía precisamente que se cumplían los acuerdos

bien decía el primer punto que modifiquen los planteamientos de la primera propuesta rpt para el personal encuestador inspector que ha presentado la mesa sectorial

como pone de manifiesto la lectura de las diferentes actas que recogen lo realizado lo acordado y lo debatido en las mesas sectoriales después decía

y la creación de una comisión técnica para evaluar las cargas de trabajo bien

allá por el ocho de julio del año dos mil dieciséis elaboró tres alternativas en base a una de las cuales se elaboraron un conjunto de propuestas a mi juicio

son analizadas en diferentes comisiones sectoriales mesas sectoriales convocadas a este efecto le cito son cinco marzo dos mil diecisiete veinticinco de abril de dos mil diecisiete nueve de noviembre de dos mil diecisiete veinticinco de enero de dos mil dieciocho veintidós de febrero de dos mil dieciocho

lógicamente en el debate en la negociación sobre la rpt además de las cuestiones relativas a su estabilidad a su discontinuidad que es lo que había dicho las sentencias de la jurisdicción laboral se incorpora otras cuestiones como el centro de trabajo

y usted seguro que en fin los representantes sindicales le pueden dar testimonio de ello

importantísimo en el ámbito de los perfiles lingüísticos no le voy a decir porque sería ilegal que lo dijera que se ha hecho un traje a medida pero usted me entiende verdad no se lo voy a decir porque

no se puede demorar más una cuestión que desde el año dos mil doce en que se dictaron las últimas

se ha ido elaborando una rpt que se aprobó el martes pasado en consejo de gobierno por tanto la rpt ya está

ambos hablan de la convocatoria de una ope de consolidación bien

la rpt es un instrumento vivo cambiante evolutivo que se puede retocar se puede adaptar pero ya tenemos la referencia que nos va a permitir optar ahora por la consolidación pero la consolidación de empleo también sabe usted que requiere un instrumento legal para ello y ese instrumento legal tiene que ser necesariamente la ley de empleo público

resumidamente el gobierno está dando cumplimiento cabal a los contenidos de ese acuerdo en el marco de lo acordado entre el año dos mil nueve y dos mil once con la representación sindical

señor erkoreka ha dicho usted que cuando termina la legislatura decaen las proposiciones no de ley

una lectura crítica bueno viene a decir con que una vez que acaba la legislatura nos olvidamos de este parlamento este parlamento no ha servido para nada

los problemas no decaen los problemas se mantienen y el problema del eustat se mantiene desde hace varias legislaturas ya varias legislaturas

compromisos yo cambiaría esos aplausos por abucheos si usted hoy se compromete

activar la negociación con todos los sindicatos para llegar a un acuerdo de verdad con ellos y no intentar imponer condiciones que los sindicatos están rechazando y que la plantilla está rechazando porque si la plantilla estuviera contenta con la labor que están haciendo ustedes

entiendo que para usted es molesto esto es molesto primero porque lo ha dicho usted hay actuaciones que vienen de legislaturas anteriores y usted no tienen nada que ver

aquí la responsabilidad recae en quienes dirigen el eustat y en quienes están en la viceconsejería de función pública el problema que tiene usted

eso significa que los criterios de actuación que se aplican en su departamento respecto a la gobernanza pública son también los de que alguna manera rigen en todo el gobierno y debería regir dos

cumplir la ley dos usar eficientemente los fondos públicos cumplir la ley usted ha dicho

diciendo que había que regularizar las necesidades permanentes de personal que tuviera

y las necesidades permanentes van más allá de trabajar de tres a seis meses usted ha dicho que hay una rpt esa rpt cuenta con el rechazo de todos los sindicatos

una nueva ley no es cierto el estatuto básico de empleo público estatal les permite hacer un concurso sí se lo permite porque lo permite expresamente pero además aquí tenemos que hacer referencia al uso eficiente de los fondos públicos

ahora mismo el gobierno está gastando más de tres millónes de euros en subcontratar encuestas fuera

más de tres millónes de euros gastados en subcontrataciones mientras tienen a una plantilla de cien personas trabajando como máximo de tres a seis meses

no es un uso eficiente de los recursos públicos y por lo tanto tenemos que denunciarlo tenemos que denunciar que no es una buena forma de gobernanza pública externalizar ahora mismo las encuestas en el eustat cuesta el doble que pagar a las trabajadoras públicas las trabajadoras con dos millónes de euros de masa

es decir cuesta externalizar exactamente el doble y eso es lo que tenemos eso es lo que tenemos

no pretendo de alguna manera echarle encima a la plantilla la plantilla ya está enfadada los sindicatos están enfadados no están haciendo ustedes su trabajo de

buscar acuerdos buscar consensos y hay un problema hay un problema real que afecta a personas cuando he hablado del material fungible

que había en los presupuestos anteriores de dos mil diez pero en la práctica en la realidad ahora mismo

no está tratando a estas trabajadoras como se merecen después de veintisiete años de trabajo y yo lo que quiero es que usted se comprometa en buscar una salida a esta situación gracias

eskerrik asko legebiltzar buru andrea señor becerra para no venir a arrancar aplausos

mire me dice que lo que tiene que hacer lo que quiere lo que persigue de este gobierno es arrancar un compromiso para que aborde una negociación que desemboque inexorablemente en un acuerdo claro para eso el parlamento puede suplantar directamente a la mesa de negociación fijar las condiciones que los sindicatos plantean al cien por ciento asumirlas al cien por ciento

eso sí que sería abdicar renunciar a la obligación que tenemos los responsables públicos para gestionar adecuadamente los recursos públicos si cualquier reivindicación de cualquier colectivo

lo aceptamos al cien por ciento y lo convertimos en norma jurídica eliminando cualquier negociación

quienes se ocupan de esas labores se puede prescindir perfectamente de ellas los esquemas de lo que ha sido la relación laboral entre la patronal y la representación sindical en la administración pública o en el sector público que ha tenido unos esquemas determinados no quiero decir con esto que el parlamento no tenga qué decir en relación con las condiciones de personal pero el parlamento en fin

a través de la definición del marco jurídico normativo de la función pública no a través de la intromisión

de las actuaciones de las mesas y de los foros en los que se lleva a cabo la negociación colectiva fijando objetivos fijando ratios y estableciendo exactamente cuál tiene que ser el punto de llegada cuál tiene que ser el horizonte al que se tiene que llegar porque es que si fijamos el horizonte de llegada

perfectamente establecida pues no se va a molestar a abordar una negociación en serio

mutuas y de aproximación de posiciones por definición

y usted o acepta el cien por ciento de lo que yo planteo o yo no me muevo porque vuelvo a plantear una iniciativa del parlamento

dentro de lo que es el esquema de los regímenes parlamentarios legítima no se lo voy a poner en cuestión

la función la encomienda y la labor que tiene cada institución en relación con esta materia me dice usted que la labor de un gobierno en relación con este y otros asuntos es doble primero cumplir la ley y en segundo lugar garantizar un uso eficiente de los recursos públicos yo estoy absolutamente de acuerdo con usted también

también que se cumplan los acuerdos pactados con las formaciones sindicales bueno

todos los pasos que ha dado el gobierno precisamente están en la línea de cumplir la ley

con el respeto a los principios de igualdad mérito y capacidad pero eso es lo que pone la ley es lo que pone la ley es posible que no les guste a muchos que una consolidación tenga que pasar necesariamente por una clarificación del panorama

todo eso hay que hacerlo me dice usted que una ope de consolidación puede hacerse en el marco

lea con atención el estatuto básico del empleo público y los términos temporales a los que limita esa habilitación

hace falta una habilitación expresa que hoy por hoy en este momento no existe y si hacemos una convocatoria sin esa habilitación nos podemos encontrar con más recursos de terceros interesados

y tantas expectativas siempre hay que darlos con mesura y con ponderación luego me habla del uso eficiente de los recursos públicos y hace una cuenta una cuenta que bueno es una de las que se pueden hacer porque en fin aquí sumando partidas cogidas de aquí y allá lo que ustedes gastan lo que podrían gastar y demás

que lo acordado con los sindicatos el año dos mil once

se produjeran las ciento uno sentencias que antes hemos comentado inmediatamente después se alcanza un acuerdo que dice que el compromiso del gobierno pactado con los sindicatos es asumir por personal fijo el desempeño de la actividad ordinaria del eustat no de toda la actividad estadística del eustat

asumir por personal fijo el desempeño de la actividad ordinaria del eustat y esto ahora con la rpt personal fijo discontinuo pero fijo no ya se está haciendo

el compromiso asumido con la representación sindical el año dos mil once esto ahora con la rpt se está haciendo personal fijo elaborando la actividad ordinaria del eustat esto es lo que se ha cumplido por tanto se cumple la ley la eficiencia se garantiza y encima estamos

gracias señora presidenta señores consejeros señora consejera el dos de mayo la comisión europea presentó su propuesta de presupuesto

deben afrontar la salida del reino unido de la unión europea esta salida del reino unido que es uno de los principales contribuyentes netos estiman

una parte de este agujero se afrontará con recortes y dónde se recortará si el setenta por ciento del presupuesto comunitario se destina a la política agraria común y a los fondos estructurales es inevitable que estas dos sean las que sufran los recortes y así lo ha planteado bruselas recorte de entre el cinco por ciento y el diez por ciento para estas partidas reducir aproximadamente en veinticinco mil millónes de euros los

asignados actualmente a la agricultura además de reducir un cinco por ciento los fondos de la pac la comisión europea

a lo que hay que sumar casi un quince por ciento de reducción de los fondos destinados a la política de desarrollo rural señora presidenta un momento
cuánto tiempo me ha puesto diez minutos diez son diez sí sí no es que me ha parecido que ha pasado mucho

rural luego hay quienes apuntan que hay que sumar a estos recortes la inflación a lo largo de todo el periodo presupuestario un dos por ciento anual

una pérdida real del diecisiete por ciento de las ayudas es verdad que hay opiniones y criterios diversos pero todos van a la baja todos apuntan recortes y van desde el cinco por ciento al treinta por ciento es verdad que queda un año para buscar alianzas y negociar pero tenemos que pensar y ya tenemos una larga experiencia en estas negociaciones que la

un horizonte negro presentar un escenario gris llegar a la negociación

aunque quede por debajo del actual nos parecerá un éxito eso ha sido así en todas las propuestas y nos vamos dejando muchos pelos en la gatera

con la consiguiente pérdida para el sector primario además de los recortes de pagos directos y pac y desarrollo rural la comisión europea quiere que el componente verde o ecológico de la pac sea mayor en el futuro que en la actualidad

lo avanzaba en su comunicación sobre la nueva pac de noviembre del año pasado y parece que se confirma según algunos borradores de reforma que se han filtrado

se amplia los beneficiarios de pagos directos deben seguir cumpliendo las normas de condicionalidad buenas prácticas y medioambientales pero el listado de condiciones

tendrán que cumplir un total de trece exigencias reglamentarias y doce buenas condiciones agroambientales de las que cinco son nuevas todo esto está muy bien

pero cuando nos falta la transformación difícilmente podremos repercutir este esfuerzo y no recuperamos

nos quedamos con la parte más complicada más costosa y que menos valor

toda esta situación está generando un amplio rechazo en el sector agrícola y ganadero no les salen las cuentas especialmente en nuestra comunidad autónoma porque efectivamente carecemos en muchos sectores sus sectores de transformación la comisión europea pretende acometer un recorte de más de cuarenta mil millónes para los próximos seis años

son producir cada vez más con normas más estrictas y con menores protecciones a los agricultores y ganaderos y esto es sino imposible muy muy complicado usted sabe señora consejera que en muchas ocasiones es cambiar dinero de un sitio a otro con rentabilidad casi nula perdida es normal que los agricultores y ganaderos se sientan los paganos de despropósitos históricos como el brexit o que deben asumir los costes para frenar a las personas que quieren entrar en europa lo sienten como un mal menor

se sienten como un mal menor un efecto no deseado pero que nadie

coto a los recortes que les afectan la pac ha permitido y permite que disfrutemos de los alimentos más sanos más variados más seguros y de más calidad del mundo menos pac significa menos europa la política agraria común es desde su creación uno de los pilares de la construcción europea

va perdiendo peso y esto es preocupante esta

en el treinta por ciento del presupuesto europeo cuando en sus orígenes significaba más del cincuenta por ciento esta propuesta también propone recortar los fondos de cohesión y los fondos de desarrollo rural fondos imprescindibles para frenar el despoblamiento de las zonas rurales

compartimos los aspectos que se recogen en el documento visión de futuro de europa que ustedes presentaron

y dicen que es necesario el mantenimiento de los dos pilares actuales ayudas directas de la unión europea y la política de desarrollo rural

la creación de un tercer pilar financiado por bruselas como mecanismo de apoyo ante posibles crisis de los mercados mayor subsidiariedad y flexibilidad de las normas para la gestión de la pac por parte de las regiones al objeto de dar

no sujeto a normas rígidas y que motive y propicie la incorporación de jóvenes agricultores y ganaderos e impulsar la agroindustria

afrontar con el recorte propuesto y nosotros le queremos preguntar si ustedes como gobierno están comprometidos o se comprometen a incorporar partidas presupuestarias para poder llegar y hacer todo esto que ustedes han propuesto y proponen hay que recordar que el treinta por ciento de la renta de los agricultores

este recorte en las ayudas del desarrollo rural dificulta la competitividad del sector agrario y su posicionamiento frente a las importaciones de países terceros

y resignado creemos que ha perdido o está perdiendo la pasión esencia de esta actividad si la actividad agraria y ganadera se mantiene en muchas situaciones críticas es porque un porcentaje

está basado en la pasión que nuestros agricultores y ganaderos sienten por su actividad y por su entorno por lo tanto creemos que tenemos un trabajo importante desde el grupo popular señor consejera queremos mostrarle nuestra preocupación por los efectos que esta situación puede provocar en el sector agrícola y ganadero de la comunidad autónoma vasca hoy el sector de la comunidad agrícola y ganadero de la comunidad autónoma está en una situación

en tiempo que me queda para jubilarme y calculando la mínima inversión

y esto pasa porque no ven futuro en general esta también repercute en la baja incorporación de jóvenes y nosotros señora consejera

cómo afronta cómo vamos a afrontar desde euskadi esta situación de recorte sabemos que tenemos un año para negociar como le decía que desde luego no tengo ninguna duda que el gobierno de españa arropado por todas las comunidades

los mejores porcentajes para nuestro país pero seguro que vamos a perder algo estamos casi convencidos de que algo vamos a perder y eso ya como le decía

vamos perdiendo capacidad y creo que está llevando al sector agrícola y ganadero a una situación de ser por ejemplo en álava un sector un potente está quedándose en una situación

probablemente se va a reducir de manera importante y eso señora consejera nos preocupa y me gustaría saber cuál es el posicionamiento del gobierno
ante este nuevo escenario que tenemos de recortes de la política agraria común eskerrik asko lópez de ocariz andrea

sin embargo sí voy a repasar el trabajo que se ha realizado por parte del gobierno vasco en este caso ante el nuevo escenario presupuestario que se está preparando en europa

ocasiones hemos hablado hemos solicitado hemos exigido que se nos permita asumir un mayor nivel de gestión un mayor nivel para trabajar

también en el resto de fondos estructurales de fondos de inversión que tienen que ser a nuestro juicio más regionalizados hablamos del reconocimiento y del respeto a las competencias en este caso de nuestra comunidad autónoma porque creemos

especialmente en las medidas de desarrollo rural podríamos hacerlo mucho más adecuado a nuestra comunidad también lo podrían hacer otras comunidades que son realmente diferentes

en ningún caso se ha atendido a esto siempre cae en saco roto esta solicitud pero diría que en cualquier caso el gobierno ha trabajado

hemos trabajado para que se materialice esa solicitud pero también hemos trabajado para que desde nuestros márgenes de actuación podamos hacer llegar a la comunidad europea a la unión europea cuáles son nuestra perspectiva respecto a estos nuevos presupuestos en ese sentido dentro de ese nuevo marco presupuestario desde el gobierno vasco se envió un documento

de europa de la plurianualización de ese presupuesto plurianual se envió en dos mil diecisiete ya es decir el pasado año lo saben ustedes diez criterios diez propuestas concretas para elaborar este presupuesto hacía referencia a un conjunto de actuaciones pero también hacía referencia a la política agraria comunitaria

parte de ese documento hablábamos de que debían existir más recursos para una mejor europa para que una política de cohesión cumpla los requisitos que se ha fijado desde luego debe existir más suficiencia tiene que haber suficiencia presupuestaria y tiene que ejecutarse de una forma hablábamos de una cohesión territorial con el objetivo de conseguir oportunidades equivalentes para todos los ciudadanos y ciudadanas de la unión vivan residan independientemente

zona rural que todos y cada una de las personas que vivimos en la unión europea tengamos

suscribimos los planteamientos de la comisión planteados en la comunicación uno sobre el futuro de alimentos y de la agricultura en relación a la promoción de un mecanismo denominado de verificación rural y la aplicación de esa denominada también lente rural

en el fomento de la prosperidad rural queda así recogido hemos propuesto además a bruselas una política claramente enfocada al territorio que mantenga como objetivos

de aquellos problemas en el ámbito rural y pesquero de forma concreta aquellas zonas que acusen problemas ligados a la globalización aquellos que acusen problemas asociados a la liberalización de mercados en particular además

en este planteamiento además incidimos en la mayor consideración en la mejor consideración de las regiones

especialmente relevante en este caso en las políticas de desarrollo rural como usted bien ha citado en este sentido además solicitábamos la regionalización de todos esos fondos de inversión y los fondos estructurales de tal manera que la proyección regional y el ámbito de competencias que en cada región

tengamos capacidad las podamos llevar a cabo de forma directa a nuestro juicio conseguiríamos resultados más eficaces más directos más positivos además trasladamos una valoración muy positiva del desarrollo del sistema de la estrategia de especialización inteligente porque suponía además una herramienta clave también en este sector y usted hacía referencia

sector agrario nuestro sector pesquero profundizando además procesos de coordinación internos además de esos criterios generales

esos criterios además han sido como siempre consensuados con las diputaciones forales

de los agentes del sector afectado establecíamos los siguientes objetivos el rejuvenecimiento del medio rural tanto de activos agrarios como no agrarios

bajo el modelo de agricultura familiar el fortalecimiento del papel

en toda la cadena agroalimentaria la mejora del medioambiente y la lucha contra el cambio climático el fomento y apuesta decidida por lo natural y la alimentación saludable la preservación del espacio rural como elemento fundamental que vertebra el territorio de euskadi y configura además su paisaje

en esos ámbitos y por último la mejora del nivel de bienestar de la población rural como factor sustancial para la cohesión social y la cohesión territorial el gobierno vasco ha hecho el trabajo que le correspondía y me gustaría señalar que la posición defendida desde nuestro departamento siempre ha nacido como decía del consenso con los agentes implicados y también los va ser siendo a futuro en cualquier caso

yo creo que todos y cada uno de los agentes implicados tenemos que hacer nuestro trabajo pero quiero insistir sobre todo quien ejerce la responsabilidad y quien ejerce esa conexión directa
con la unión europea en estos momentos eskerrik asko eskerrik asko tapia anderea

señora consejera me está dando la impresión de que nos movemos en dos planos diferentes el que usted nos ha explicado aquí

el real de la actividad agrícola y ganadera usted se mueve en el plano político

usted gobierno pero ahí no nos vamos a meter y

oiga usted haga lo que tiene que hacer para que yo agricultor y ganadero el que hace la actividad vea resultados y todo eso que usted dice que hace no llega eso es así eso es real o sea hoy el tejido agrícola ganadero el sector

desilusionados que no ven futuro y por lo tanto

alquilar la tierra o la granja para seguir esta actividad es que el futuro a corto plazo es muy oscuro entonces usted se pierde en la actividad que usted desarrolla me relaciono no yo quiero ir también quiero estar sentado

ese es su posicionamiento pero después hay una actividad

que ve cómo le van a bajar las ayudas pac que ve que tiene más exigencias a la hora de producir y que su renta el treinta por ciento de su renta

conforman el treinta por ciento de la renta del sector agrícola entonces señora consejera a mí me parece muy bien que usted pelee por estar en aquellos sitios que dice que quiere estar pero es que estamos hablando de otra cosa es cómo se traduce esto

y ustedes como gobierno qué compromiso van a adquirir con estos sectores que van a ver recortados sus ayudas

de producto muchos años no se ha avanzado absolutamente nada qué estamos avanzando en el sector del cereal

es tremendo nuestro producto va a otras comunidades autónomas a otros sitios por lo tanto señora consejera yo creo que nuestra obligación es trabajar pero intensamente por el mantenimiento de la actividad agraria y del medio rural un medio rural y una actividad agraria vivas

y para esto tenemos que diseñar instrumentos compatibles con la pac y con su aplicación que incorporen valor añadido que contribuyan al mantenimiento de la actividad

de transformación a nuestros productos porque hacemos la parte más compleja que más coste tiene y que menos aporta por lo tanto señora consejera esto que llevamos tantísimos años repitiéndolo desde luego

estamos como estábamos además tenemos la obligación

que tanto han contribuido y que desde sus actividades

una oportunidad y es así una oportunidad para hacer una estrategia de instrumentos compatibles con la pac para
revitalizar y dinamizar el sector agrario y ganadero eskerrik asko lópez de ocariz andrea

cuando quien tiene que conseguir que el recorte de la pac para el estado español sea mínimo persona de su mismo partido político y usted me esté achacando como gobierno vasco que nosotros tenemos que complementar algo que ya usted da por supuesto que va a ser un recorte muy importante como gobierno vasco puesto que no me puedo sentar a negociar como usted dice que reclamo porque es nuestra competencia por cierto como no me puedo sentar a negociar directamente

en esa mesa en la que nos sentamos con la señora garcía tejerina que no me cabe duda por otra parte que hará todo lo posible para que ese recorte sea el mínimo es ahí donde yo puedo hablar y donde hablaré como gobierno y donde expondré todas mis razones la responsabilidad dado que ese principio de subsidiariedad que estamos de forma constante exigiendo no solamente por parte del gobierno vasco sino todas las regiones todas las comunidades autónomas en este caso en el estado español que nos sentamos en la conferencia sectorial no llega y no se acepta cosa que por cierto la pac

y el papel de las regiones cosa que no se quiera aceptar por parte del estado español pues bueno es un papel difícil el suyo lo entiendo pero no me pida que yo complemente

debe realizar la señora ministra porque yo no puedo realizarlo a partir de ahí me da la sensación de que usted debe estar con

una parte del sector agrario que es cierto que tiene dificultades pero quizás se olvida de una parte del sector que está sufriendo una transformación para bien muy interesante que se está produciendo una industria alimentaria en estos momentos que está creciendo que está generando empleo usted se olvida de todo eso eso es una realidad también

estamos hablando de un presupuesto comunitario estamos hablando de que el gobierno vasco ha

las condiciones que considera que se tienen que llevar a cabo en general para la elaboración del presupuesto de la unión europea en todos sus aspectos pero también para el desarrollo de la pac y a partir de ahí trabajaremos como lo hemos estado haciendo hasta ahora pero

es lo que menos le importa pero es lo más relevante por qué porque sabe usted perfectamente que en el caso del resto de las comunidades autónomas quien tiene que complementar esos fondos europeos es el estado español mientras que en nuestro caso

debe ser porque tenemos una relación similar y porque tenemos unas competencias similares sin embargo se nos niega absolutamente esa presencia luego no me ponga

en la traba ni en la dificultad no se ponga usted en la traba ni en la dificultad de tener que explicar por qué no podemos negociar directamente

por qué no lo podemos hacer dado que la complementamos de forma directa y no la complementa el estado español lo hacemos como gobierno vasco no me diga usted que tengo que negociar algo

cuando desde el estado español no se nos permite es la ministra quien lo tiene que hacer y quien tiene que pelear

nos repartirá graciosamente a todas las comunidades

porque esos recortes sean los mínimos posibles eskerrik asko eskerrik asko tapia

todos los que estuvimos allí tenemos que hacer esa evaluación además es importante hacerlo

ver cómo se pueden usar mejor los recursos que tenemos de forma eficiente y ver qué papel hemos jugado cada agente efectivamente

cuál fue nuestro papel cuál era nuestro objetivo y qué tenemos que hacer

la próxima vez sobre la feria le voy

a pesar de que era una feria cuatro punto cero de la industria cuatro punto cero tengo la sensación de que era una feria exclusivamente tecnológica porque ya sabe usted se lo he dicho en algún otro discurso que desde nuestro grupo entendemos que la revolución cuatro punto cero es algo más que tecnología es también cambio en las formas de trabajar de las personas en las organizaciones y evidentemente

no había nada de eso y también vi una feria orientada fundamentalmente al mercado alemán

que habrá que tener en cuenta de cara a digamos a nuestra presencia en el futuro pero

mi primera impresión fue que había que estar que había que estar en esa feria

cosa que no hizo por ejemplo españa habrá muchas maneras de estar y eso les corresponde a ustedes que son a la gente de su departamento que es la experta en estar en ir a ferias o en representar a nuestro país en esas ferias

que ir las empresas y demás pero el objetivo de la evaluación sí creo que tiene que ir orientado

si se han cumplido los objetivos comerciales por un lado si se han cumplido los objetivos institucionales por otro los objetivos

establecer nuevas relaciones comerciales y a nivel institucional exactamente igual ustedes desarrollaron contactos con diferentes regiones incluida la que era la protagonista méxico tendrán que evaluar cuál es el resultado de esas gestiones pero

si los resultados no fueran buenos y habida cuenta de que tenemos que estar sí le pediría que de cara

dos factores fundamentales uno dos criterios de gobernanza como le he dicho antes al señor erkoreka uno

es decir si vamos allí pero no conseguimos más contratos o tenemos que estar pero digamos el resultado práctico no es el que esperábamos racionalicemos nuestra presencia allí y eso también tiene que ver con el parlamento y con la delegación del parlamento y la segunda cuestión es seamos transparentes

hemos conseguido qué contratos se han conseguido qué presencia qué

y además a la hora de establecer qué empresas van a qué empresas apoyamos qué empresas nos acompañan en ese viaje seamos transparentes en la selección

es decir hay que sembrar y regar para después poder recoger y yo creo que es una de las cosas que estamos haciendo cada vez que asistimos a un evento de estas características la presencia de euskadi en hannover messe fue muy amplia fue el stand de

con el industry cuatro punto cero pero también había empresas particulares más de veinte con sus propios stand

pero sí le voy a hacer un breve análisis de unos primeros resultados que hemos evaluado unos primeros de nuestra presencia sobre todo tecnológica e institucional que es lo que había

diversidad de productos diversidad de análisis su primera evaluación a la espera de un detalle es muy positiva en cuanto a los contactos que realizaron tanto a nivel tecnológico

la aceleradora de emprendimiento bind cuatro punto cero también estuvo presente en el

ha suscitado interés en diversas delegaciones ha suscitado interés en cuanto a cooperación y en presencia de

convocatorias aquí en euskadi sobre todo en los estados mejicanos

y también aunque parezca un poco extraño en emiratos árabes la exhibición y agenda de networking de nuestras start ups allí presentes había dos

su primera evaluación también es muy positiva a la espera de ver si se traduce en algún contrato muy concreto y veremos si en esa tercera edición que se pondrá en marcha este año conseguimos atraer más start ups de esos lugares que han

su mayor interés en cuanto a atracción de inversión extranjera porque también había personas de invest

empresas extranjeras que estaban interesadas en participar e invertir en euskadi con instituciones internacionales cooperadoras para conseguir esas inversiones con el ministerio de industria alemán con la región de trentino

con la cámara de comercio de bayona también aunque esté cercana estuvo allí presente y con diversas cámaras de comercio alemanas

proveedoras de servicios de apoyo a la búsqueda de inversores con el objetivo de atraer el máximo número de inversiones a euskadi con cuatro de carácter internacional y con fondos interesados ya en invertir en esas start ups que hemos atraído en el bind cuatro punto cero a nivel institucional la agenda

intensa no llegó a ser de día completo

con el secretario de estado de méxico que además a partir de ese contacto ha realizado ya una visita a euskadi para conocernos in situ con el estado de nuevo de león con el compromiso de firmar un acuerdo para el bind cuatro punto cero y para la política clúster

avanzada de singapur con el objetivo de establecer colaboración con nuestros centros tecnológicos y un intercambio de investigadores ya tenemos un investigador ya formado en euskadi

establecimos ya la política para hacer unas misiones directa e inversa es decir de empresas alemanas hacia euskadi y de euskadi hacia alemania

tecnológico de todo lo que había por allí de promocionar la imagen de país y en definitiva de generar sinergias una evaluación más intensa la haremos un poco más adelante pero

sí gracias señora presidenta señor consejero le pregunto por los suelos para la infraestructura del saneamiento del alto nervión el veintiocho de febrero de dos mil diecisiete en la comisión de presupuestos

por parte de ura compra imprescindible para desarrollar el proyecto

el seis de noviembre de dos mil diecisiete en la comisión de presupuestos dos mil dieciocho le volvía a hacer la misma pregunta y me decía como no hay proyecto no se puede expropiar jurídicamente es imposible usted no se entera

sabiendo señor consejero que estaba el proyecto en alegaciones y por lo tanto había un proyecto aprobado proyecto que el doce de marzo de dos mil dieciocho recibe la declaración de impacto ambiental favorable proyecto que

el informe de viabilidad el dos de mayo hace pocos días el ministerio de medio ambiente publicó en el boletín de la unión europea el anuncio previo de adjudicación de las obras de la red de saneamiento del alto nervión

los presupuestos generales de españa para dos mil diecinueve

partido va a apoyar en madrid espero también los resto de los grupos

licitación será el uno de agosto próximo las obras podrían comenzar el dos mil diecinueve y el sistema podía entrar en funcionamiento el dos mil veintitrés señor consejero además el veinticinco de abril a raíz de una moción presentada por el grupo popular en las juntas generales de álava por unanimidad se instaba al gobierno vasco y a ura

comiencen a la mayor brevedad posible los trabajos para la obtención de los terrenos

y señor consejero dos meses con impacto

sobre la mesa tuvieron también información previa ya lo sabían han comenzado los trabajos para la obtención de los terrenos qué ayuntamientos les han hecho donación o han puesto los terrenos a disposición cómo está la relación con la diputación foral de álava

a tramitar de qué características cuál es su planificación para poner esos terrenos a disposición de esta infraestructura hidráulica

gracias presidenta señora lópez de ocariz efectivamente es una buena noticia que después de tantos años

contraídos en mil novecientos noventa y cuatro como usted decía el pasado dieciséis de marzo se publicó en el boletín oficial del estado la declaración del impacto ambiental de saneamiento y depuración de la cuenca alta del rio nervión

finalizó el periodo de alegaciones de información pública sobre los proyectos que lo conforman falta ahora

aquellas que sean pertinentes y apruebe definitivamente los proyectos constructivos

es también cierto que el veintiocho de abril y dos de mayo de publicaron en el diario oficial de la unión europea

su contrato de servicios para el control vigilancia y coordinación de seguridad y salud como usted sabe el objetivo de estos anuncios es reducir los plazos de redención de ofertas y se prevé como fecha de licitación

esta es la situación que tenemos a día de hoy el ministerio está respondiendo a nuestras demandas y dando los necesarios y como sabe también esto está supeditado a disponer de presupuestos que permitan acometer estas obras por parte del departamento

es del todo necesario contar con los proyectos definitivos una vez que se nos comunique la aprobación

nos pondremos lógicamente con toda diligencia a hacer nuestro trabajo y le aseguro que los terrenos van a estar listos y disponibles antes de que se adjudique la ejecución de las obras

señor consejero más de treinta años detrás de esta infraestructura las gentes del lugar casi no recuerdan el nervión limpio

ochenta millónes de euros un lujo señor consejero usted que tanto invoca a la

si hay voluntad hay disponibilidad económica y el gobierno de españa ha tenido la voluntad con la colaboración del grupo nacionalistas vascos de hacer ya ha tenido esa voluntad

me puede decir cuántos ayuntamientos han puesto terrenos a disposición de ura eskerrik asko lópez de ocariz andrea arriola jauna zurea da hitza

no se preocupe usted desde la agencia vasca del agua y desde el departamento lo tenemos todo dispuesto

el proceso de obtención de los terrenos que se van a gestionar mediante expropiación

necesitamos el proyecto definitivo es así no es que lo diga yo

es así las dos depuradoras y la red de recolectores afectan a un total de trescientos setenta y cinco parcelas

la mayor parte de ellas son de propietarios privados

y para acelerar el proceso lo llevaremos el consejo de gobierno

que son propiedad de los ayuntamientos de amurrio ayala llodio del concejo de saratxo

de este territorio ura ha iniciado ya las conversaciones con todos ellos y todos han mostrado su voluntad de poner sus parcelas a disposición de gobierno vasco mediante convenios de colaboración u otras modalidades de cesión para abonar el pago de las expropiaciones como usted sabe

en el presupuesto de este año la cantidad de dos coma cinco millónes de euros que ya conoce usted así que por nuestra parte tenemos todo preparado para que las obras se inicien

los dote presupuestariamente y los adjudique y yo me alegro que por fin estemos en una vía de que esto pueda solucionarse

abonar el ministerio para hacer frente a un compromiso que asumió hace treinta años si hacemos la cuenta de ochenta millónes entre treinta haga usted la cuenta

agencia vasca del agua y esa jerarquización realizada de todas las infraestructuras pendientes de ejecutar en álava que hacen en dos horizontes dos mil dieciséis dos mil veintiuno y dos mil veintiuno dos mil veintisiete

coste beneficio de la inversión pública entendiendo como beneficio la corrección de las mayores deficiencias en el estado ecológico y población afectada

para dentro de diez años horizonte dos mil veintiuno dos mil veintisiete a pesar

por unanimidad de los tres grupos nacionalistas vascos bildu y grupo popular aprobaron una moción instando a ura gobierno vasco a dar una solución a su problema de saneamiento

más de veinte años pendientes y le preguntamos cuál es la solución que ura está trabajando para el saneamiento de artziniega qué criterios

sigue el proyecto del año dos mil trece en vigor o se está trabajando en otra solución

gracias señora presidenta señora lópez de ocariz efectivamente como usted conoce el proyecto denominado solución

está en el acuerdo marco que firmamos con la diputación foral de álava en julio del año pasado y horizonte de ejecución

y otro de disposición de recursos es verdad y yo entiendo y comprendo que todas las necesidades de la ciudadanía son importantes

convenio marco se acordaron las actuaciones que se debían de acometer antes como son las depuradoras de aguas residuales de agurain o de oion y se planificó para el siguiente periodo otros proyectos

que el abastecimiento y el saneamiento no es una competencia del gobierno vasco ni de ura es una competencia directa de las administraciones locales

en estas cuestiones básicamente con el objetivo de mejorar la calidad del agua en general en euskadi

como en las actuaciones de abastecimiento el agua de los ríos y las masas generales de aguas volviendo a su pregunta otros criterios básicos para buscar

y aplicar principios de recuperación de costes de las inversiones mediante las tarifas de servicio y esto nos lleva a defender el criterio general

un tratamiento centralizado de los vertidos urbanos frente a soluciones autónomas

y esto pasa por potenciar soluciones a nivel comarcal de saneamiento mediante soluciones a nivel local y ello por pura eficacia y eficiencia

usted se ha comprometido su departamento está comprometido y creo que eso ha quedado claro y lo han firmado en distintos documentos por lo tanto

usted es el responsable de ejecutar las obras que ha firmado en un convenio sin más artzineaga mil novecientos habitantes aproximadamente está pagando el ayuntamiento un canon de vertido anual de aproximadamente dieciocho mil euros cuando ustedes hablan de balance

hablan porque para el ayuntamiento el coste está claro

el coste año tras año está claro el coste de la no ejecución

entiendo por beneficio pues la corrección de las deficiencias del estado ecológico

tienen en cuenta el coste como le decía para el ayuntamiento de la no ejecución de la infraestructura dinero del ayuntamiento también es dinero público como el suyo y también

pero no puede decir no pago tiene que pagar el canon señor consejero los ciudadanos y además

y creo que es que es pleno tras pleno donde sale esta cuestión porque además tienen un desconocimiento desde el año dos mil trece de cuál es la realidad de su proyecto si hay alguien mirándoles les está mirando alguien alguien

es que realmente es llamativo el desconocimiento ni el alcalde ni los portavoces de los grupos nadie tiene conocimiento o por lo menos allí no se traslada

como le digo tiene la oportunidad de leer las actas el desamparo que se ve es amplio

le he dicho es que no siendo competentes hemos asumido la ejecución de esta y otras obras en auxilio a ayuntamientos o mancomunidades como hacemos en otras ocasiones dentro de la capacidad que podemos tener

hay dos posibles soluciones una solución autónoma otra de conexión mediante colectores con la depuradora de güeñes desde el punto de vista de la solución cuál es la que entendemos desde ura que es mejor la conexión con colectores con güeñes

el proyecto definitivo y habrá que hacerlo también desarrollando el convenio en la medida de lo posible de acuerdo con la diputación foral de álava que para eso hemos firmado ese convenio marco

las infraestructuras recogidas en él y lógicamente usted me dice es que esto va al horizonte

porque estamos ordenando los compromisos que vienen de la historia

establecer una planificación que nos haga volver a incumplir

pues tenemos que hacerlo de forma planificada teniendo en cuenta las capacidades reales de inversión que podemos tener de cara al futuro porque claro usted hace unos planteamientos que van en contra de esa planificación adoptada con la diputación foral de álava y quiere usted que se incluya en el primer periodo el abastecimiento del alto baias y quiere usted que se incluya en el

periodo hasta el veintiuno se incluyan cuarenta y dos y que queden ocho para el segundo eso no es serio señora lópez de ocariz

dentro de las líneas de actuación básicas ya identificadas en el pacto está la siguiente favorecer que todos los niños y niñas puedan recibir servicios de atención infantil accesibles asequibles y de calidad

ha puesto de manifiesto el impacto positivo que una atención infantil de calidad tiene en las perspectivas de desarrollo de futuro de la infancia

alcanzan posteriormente mejores resultados educativos por ello como se ha señalado previamente las políticas de inversión en la infancia y de apoyo a las familias ponen de forma creciente el énfasis en la atención temprana y en el desarrollo de servicios de atención infantil accesibles

asequibles y de calidad ha de formar parte de una política verdaderamente eficaz en favor de la igualdad de oportunidades si se tienen en cuenta las bases de aprendizaje así como el origen principal de las desigualdades que se remontan al periodo preescolar este departamento

tiene el compromiso de garantizar la igualdad en el acceso a la educación mediante el impulso de un sistema educativo que contribuya a superar los obstáculos socioeconómicos garantizando la cohesión a estos efectos con el objetivo de garantizar la universalidad del sistema

y para ello removiendo cuantos obstáculos socioeconómicos pudieran existir en aras a una educación de calidad en igualdad de condiciones y de una manera justa y equitativa

tal y como he puesto de relieve en mi primera intervención de este pleno el desarrollo de modelos de gestión de los servicios complementarios fundamentalmente servicio de transporte y comedores escolares

o el refuerzo de medidas de conciliación familiar y laboral como puede ser a través del sistema establecido y bonificaciones a la matrícula de las haurreskolak modulado en función de las rentas de las familias misio nagusi bat aurrera eramateko jaio zen haurreskolak partzuergoa hain zuzen ere

adicionalmente debemos seguir reorientando las políticas educativas y profundizar en la construcción de un sistema escolar inclusivo y coeducador capaz de garantizar la equidad y de compensar las dificultades del alumnado en situación de desventaja social y económica sin duda estamos de acuerdo que para un mejor cumplimiento de los desafíos a nivel de política familiar y demográfica

son necesarias medidas complementarias como son la bonificación de cuotas a las familias de rentas bajas pero abordadas desde una perspectiva integral

que se aprobará próximamente en este mes de mayo eskerrik asko

a estos efectos se continuará reforzando las medidas de conciliación a través del sistema establecido y de las bonificaciones a la matricula del consorcio haurreskoak en función de la renta de las familias

teniendo en cuenta la demanda real existente en la actualidad y cuidando la adecuación de las haurreskolak a las necesidades de las familias y también a garantizar los recursos públicos que permitan seguir avanzando en la calidad y la calidad de nuestro sistema educativo medidas

o este año cumpliendo el mandato de esta cámara en lo relativo al conocimiento y promoción de la naturaleza estratégica del consorcio haurreskolak y su labor

se ha realizado una campaña de promoción del calendario en matriculación de haurreskolak una campaña específica y propia

el próximo quince de junio se procederá a la publicación de listas provisionales y tras un periodo de reclamaciones y subsanaciones y desistimiento

las resoluciones que le acabo de citar no son medidas aisladas sino que forman parte de un conjunto de noventa y cinco resoluciones aprobadas en el debate anteriormente citado

con un enfoque integral y visión interdepartamental e interinstitucional para la adecuada toma de actuaciones y coordinación de las mismas

se procedió entonces a la baremación de las solicitudes que en su momento excedían el ratio establecido tal y como dicta el decreto eskerrik asko

durante el periodo de matriculación del curso dos mil diecisiete dos mil dieciocho la normativa en vigor efectivamente era el decreto treinta y cinco barra dos mil ocho de admisión

por la que se establece el calendario común de presentación de solicitudes y plazos de admisión

tal y como se refiere en su artículo dos la continuidad de los estudios en los diferentes niveles y etapas en el mismo centro se garantizará de forma automática y por tanto no requerirá solicitud de admisión salvo cuando se trate de acceder a un aula de dos años la continuidad del alumnado de dos años en aulas de tres años en centros privados concertados quedará garantizada siempre que participen en este proceso de admisión

el número máximo de plazas que pueda admitir las aulas de tres años autorizadas en dicho centro al inicio al proceso de admisión regulado por esta orden es decir en respuesta a su pregunta

y en base a la normativa en vigor que acabo de mencionar pudo mantener a todos los alumnos en el paso a tres años sin necesidad de baremar porque tenían la autorización para un aula adicional

aurkeztu zenean el decreto uno barra dos mil dieciocho

en la comisión de educación un decreto para nosotros y para nosotras suficientemente

no estamos hablando solamente de un decreto ordinario del gobierno sino que estamos hablando del

ordena esaten duen bezala cuando para un determinado nivel y modelo lingüístico el número de solicitudes sea mayor que el número de plazas el órgano encargado es el que debe proceder a la baremación de las solicitudes de acuerdo con las normas establecidas en el decreto treinta y cinco barra dos mil ocho entonces lo que queríamos saber y lo que le volvemos a preguntar es si

así se aclara un poco más dándole detalle del nuevo decreto de admisión que sustituye al ya derogado del dos mil ocho es decir

estaba hecha con el dos mil ocho pero ahora tenemos un nuevo decreto entonces el proceso de admisión de dos mil dieciocho en curso se rige en base al nuevo decreto de admisión desarrollado por la orden del quince de enero

de manera análoga en el artículo dos de la misma establece que la continuidad del alumnado de dos años en aulas de tres años en centros privados concertados

que puedan admitir las aulas de tres años planificadas en este caso por el departamento competente en materia de educación de dicho centro al curso correspondiente el cambio

a tres años planificadas es muy importante va directamente encaminado a evitar este tipo de actuaciones como la producida en beasain

en dos mil dieciocho dos mil diecinueve beasain ikastola ha baremado tanto en dos

barrio jauna zurea da hitza gracias presidenta buenos días a todos y a todas

lectura y libros la lectura y lo que lleva alrededor

quizá cultural más potente que impregna todos los órdenes además de la vida quizá de las personas es decir la cultural por supuesto el ocio

sin ningún género de dudas y por eso esta iniciativa entroncando con alguna iniciativa que hemos podido analizar y entender es una iniciativa de futuro elemento clave de la política cultural que como decía antes impregna todas las demás y es que la cámara del libro de euskadi que agrupa librerías distribuidoras editoriales empresas de artes gráficas especializadas en la producción de libros elaboró

vasco lo que denominaban plan vasco de fomento del libro y la lectura

en ese sentido y por eso recogemos esa aportación porque el propio plan vasco de fomento de la lectura y

lo ponían a disposición de la sociedad del país vasco ese plan y además decían que esperamos que en parte o en su totalidad las administraciones públicas de nuestra comunidad autónoma las administraciones en conjunto con la interpelación

hay otras administraciones posiblemente interpeladas en relación con la capacidad que tengan de fomentar

pues puedan poner en marcha en relación con las propuestas de ese mismo plan el documento es un documento muy interesante

que como usted conocerá sin duda y además hace tiempo pues

de situación del sector del sector ese que engloba vuelvo a repetir

distribuidoras editores empresas de artes gráficas productores de libros y

también hacía referencia a medidas de apoyo en ese plan o sugerencia o recomendaciones o que bueno que también iniciativas que es bueno estudiar y analizar y conocer desde luego

esa vinculación que el gobierno y la administración en este caso su departamento de cultura hace con esas propuestas y con ese análisis que hace

de lectura y de su fomento de la lectura y de la compra de libros del comercio del libro y de todo lo que la lectura lleva a su alrededor

formatos y en las nuevas expresiones además a través de las nuevas tecnologías y de los cambios también culturales en ese sentido que bueno ese es el elemento fundamental

hace mención hay otros planes hay otras iniciativas hay otras actuaciones y también nada más cerca recientemente

bien una última actuación en el ámbito del centro educativos de la competencia lectora del alumnado y de la afición a la lectura poner una parte de lo que el conjunto del hábito actuación de lo que hablamos puede ser perfectamente este plan

y de la vinculación con la lectura pero lógicamente a lo que se refiere la cámara del libro y su plan

es mucho mayor también hemos conocido y es bueno ver cómo ha habido producción última de cuestiones

de la semana pasada o de hace quince días o veinte días el informe sobre el sector del libro en españa

y que elaboró el observatorio del libro y la lectura una herramienta además que forma parte del plan

también conocimos en su momento también lo pudimos analizar en esta cámara

allá por dos mil once o la presentación hace unos años también por parte de su antecesora del programa

y que desde luego tienen que complementar toda una serie de esfuerzos que seguro

identificar las necesidades de esa petición de apoyo de libreros y editores

los editores los libreros los productores de libros y de material en torno al libro pues ya hablan de la necesidad de medidas de apoyo dentro del mundo del libro y la lectura

cuestiones es decir por un lado también de medidas fiscales eso corresponde a otros ámbitos que desde luego no cabe ninguna duda

de seguridad en relación con el combate de la piratería que

esta interpelado el departamento de cultura sino que en torno al libro

el de comercio el de seguridad cuando hablamos de estas cuestiones que tienen que ver con la piratería pues bien pero sí que hay medidas de apoyo que lógicamente

a la administración general en sus funciones de capacidad de actuación directa o en sus funciones de coordinación en relación con lo que pueden hacer de apoyo

interpelan en el ámbito educativo que hay están y hemos visto que hay herramientas nuevas pues las líneas estratégicas de desarrollo

de la cámara del libro de euskadi líneas estratégicas de desarrollo de las bibliotecas públicas con más eficiencia eso es una cosa

y de lectura pública reforzar los servicios centrales que dan soportes a las distintas redes de bibliotecas establecer acuerdos y plataformas de cooperación política de instalaciones bibliotecarias que hablan de una

dignidad lógicamente muchos son los interpelados pero en este sentido el gobierno vasco adquisición de libros en bibliotecas a través de la red librera como en otras comunidades autónomas

está la labor del gobierno vasco reforzar el perfil educativo y formativo dentro de las bibliotecas

medidas de apoyo a la producción y la comercialización consideraba necesario potenciar las ayudas a la traducción

su cobertura en otras líneas editoriales que no sean meramente literarias medidas para fomentar la inversión en el sector compra sistemática de licencias de todos los libros digitales producidos

de las editoriales líneas de crédito subvencionadas para acometer nuevos proyectos editoriales medidas específicas para el libro mantenimiento del estudio de la edición en la comunidad autónoma del país vasco y del estudio de la edición en euskera financiado por el departamento de cultura política lingüística

lo que permite conocer anualmente la situación evolución de la edición en esos ámbitos es decir líneas de actuación líneas de mantenimiento y líneas de potenciación y de creación

a la eliminación de obstáculos a la reducción de costes de transacción que encarece o dificultan el acceso a los libros por parte de los lectores para que

muy interesantes de análisis y desde luego que merecen esa reflexión que nosotros exigimos y pedimos al gobierno también

iniciativas y de medidas hablan del ya concretamente del apoyo a las medidas necesarias para el apoyo a las librerías

están necesitadas de medidas urgentes de apoyo que puedan garantizar su sostenibilidad en el futuro hablan de ejemplos de otros países

en concreto de francia pero bueno en cualquier caso hay que realizar un plan de apoyo a las librerías donde se prestigie el valor del libro y

es decir plan de créditos medidas de apoyo a la política de alquileres que posibiliten aperturas

fórmulas de colaboración con las instituciones es decir señor zupiria una serie de cuestiones que forman parte de un plan de un plan

y organizado por la cámara del libro en euskadi y que en ese sentido pedimos su opinión y qué cuestiones van a hacer en relación con el libro y la lectura muchas gracias eskerrik asko

este tema de tanto interés para su debate a esta cámara digo gracias porque comparto su interés comparto su inquietud que creo que es la de mucha gente interesada en la cultura y aprecio

la cámara del libro de euskadi con su plan vasco de fomento del libro y la lectura estamos inmersos

son cambios consecuencia de una nueva sociedad y de una nueva revolución

todos somos conscientes del efecto y las consecuencias que esto está provocando en muchas de nuestras actividades cotidianas

incluidos todos los miembros de esta cámara los docentes los creadores los ciudadanos los responsables familiares estamos siendo testigos y a la vez protagonistas de uno de los cambios más profundos que se están produciendo en nuestros hábitos de consumo en todos los ámbitos de nuestra vida

está influyendo de forma directa en los consumos culturales y en las diferentes formas en los que consumimos la cultura

el gobierno vasco en su conjunto pero especialmente a través de los departamentos de cultura y educación tiene entre sus propósitos principales fomentar la lectura

coincidimos con las otras instituciones del país las diputaciones los ayuntamientos pero coincidimos también con los responsables de las comunidades autónomas del estado español y con los responsables europeos de la cultura y de la educación estamos ante un cambio global y nos corresponde a todos estar atentos y analizar qué medidas

hay que establecer también prioridades y la nuestra está muy clara la prioridad es el fomento de la lectura más allá

en unos soportes o en otros para ello

así como la defensa de los derechos de propiedad intelectual de los creadores y autores y del apoyo al sector editorial

es un tema que va a dar para mucho y a la hora de hacer su análisis es conveniente que los responsables institucionales y políticos tengamos presentes el conjunto de políticas iniciativas y activas que se ponen en marcha desde todo los diferentes niveles institucionales y que afectan

todos los eslabones de la cadena de producción otros prefieren llamarle el sistema o el ecosistema del libro

del gremio del informe de la cámara del libro creo que también deberíamos empezar por hacer un análisis de los datos de los que disponemos son datos

pero son los que tenemos creo que son válidos aunque muchas veces las opiniones que los ciudadanos aportamos cuando nos hacen estas encuestas luego no se reflejan necesariamente en la realidad de nuestros hábitos de consumo y de nuestros hábitos culturales como punto de partida según los últimos estudios del sociómetro vasco podríamos

que el número de personas que afirma que le gusta leer ha crecido estos últimos años del cincuenta y dos al cincuenta y siete por ciento cinco puntos sin embargo el porcentaje de personas que leen

casi la mitad de la población dice leer casi todos los días y hay un dieciocho por ciento de la población que no lee nunca o casi nunca

citadas para explicar esa ausencia del mundo de la lectura son la falta de hábito o la falta de interés

así el porcentaje de personas que lee textos en papel ha bajado del ochenta y dos al cuarenta y ocho treinta y cuatro puntos y en estos catorce años casi se ha duplicado el número de personas que lee en euskera y ha crecido de forma exponencial el número de personas que lo hace en inglés

hay un nueve por ciento que dice que recoge de una biblioteca esos libros o esos textos que quiere leer y hay otros tantos que dicen que se los han bajado gratis de internet

también los que tienen que ver con los niveles de educación

que cuanto mayor es el nivel de educación mayor es la afición por la lectura y curiosamente cuanto mayor es

también es mayor ese gusto por la lectura el porcentaje de jóvenes de entre dieciocho y veintinueve años que dicen no leer justifica

entre los jóvenes y las jóvenes vascas esto en un contexto general que creo que es bastante peor que el que yo le he descrito en un contexto general en el que

si se excluyen los libros de texto y analizamos los datos relativos al otro tipo de textos veremos que el país vasco y castilla león

si incorporamos el ingrediente de los libros de texto la fotografía cambia completamente de color

y la comunidad autónoma vasca pasan a estar en las últimas posiciones son

creo que a partir de estos datos podemos hacer un diagnóstico de la situación y creo que después del diagnóstico debemos de abordar las políticas incluyendo

cómo podemos actuar en cada uno de ellos si me permite he hecho una relación de treces aspectos que influyen

en los que hoy en día se están desarrollando políticas concretas y si me da tiempo voy aunque sea los voy a citar el primero tiene que ver con la educación

desarrollar la capacidad comprensiva y el gusto por el libro en el sistema educativo y ahí no voy a repetirme la consejera de educación cristina uriarte ha presentado en la comisión correspondiente del parlamento el plan lector de euskadi

tienen también como elemento importantísimo el adiestramiento permanente y la formación del profesorado es importante también en tercer lugar

dar una importancia relevante a los contenidos creados para los soportes digitales hoy es una realidad innegable que nuestros jóvenes recurren cada vez más a consultas

por lo tanto cualquier acción destinada a apoyar la creación de textos de consulta

creemos que es una acción fundamental otro aspecto importante es el de mantener el apoyo a los escritores literaria y a la edición de libros también el apoyo a la literatura gráfica o a los textos de novela gráfica para muchos jóvenes el acceso a la lectura viene

tienen un efecto positivo en la formación de nuestros jóvenes en el vértice

están los premios literarios de euskadi que consideramos que deben mantenerse por la importancia que tienen en la promoción de los libros y por el reconocimiento que suponen para sus autores también es importante en este sentido el apoyo continuado e importante a todas las ferias

organiza en euskadi con los apoyos institucionales correspondientes y en este mapa adquiere una importancia muy relevante y muy importante la red de bibliotecas de euskadi que suma las bibliotecas municipales y las bibliotecas forales porque suponen centros de lectura

muy importantes los mercados exteriores también son importantes y son uno de los aspectos que se apoyan y se deben seguir manteniendo en ese apoyo y todo este sistema editorial debe de estar perfectamente replicado y reproducido en el ámbito digital o en el ámbito de internet eliburutegia viene a responder a esa necesidad

y la población vasca es la cuarta del estado en esos prestamos digitales a eliburutegia

una plataforma para el consumo abierto y permanente de materiales de consulta

de este sistema nos proponemos desarrollar la biblioteca nacional digital vasca

al señor consejero su información efectivamente es bueno

que el trabajo que ha hecho la aportación que ha hecho la cámara del libro de euskadi en relación con el plan de fomento del libro y la lectura ha sido recibido por el gobierno vuelvo a decir yo en la primera parte de mi intervención

de las recomendaciones de las propuestas y de las iniciativas

al gobierno también que las tenga en cuenta en relación con su actuación está claro que como decía también antes cuando estamos hablando de esto que estamos hablando del fomento de la lectura del libro de la producción la editorial

fundamentalmente pero de muchos otros porque dentro de la introducción general sobre el sector del libro de euskadi que hacía

del libro pues hablaba precisamente de las empresas y del comercio dentro de

me va a permitir la sugerencia dentro de lo que son los trece aspectos que

no tenemos mala suerte pues el papel de la librería y del librero

importante ese sector de libro es el comercio yo creo que es posible que esté recogido dentro de las organizaciones de alguno

yo creo que hay una posibilidad y lo decía antes en las recomendaciones sobre la veo una posibilidad de fomento de la lectura y formativa dentro del espacio de la librería

nuevos espacios comerciales alrededor de la librería que es muy importante desarrollar y apoyar desde las políticas públicas lógicamente como antes comentaba también cultura educación industria o

comercio seguridad en relación con la piratería bueno son elementos importantes que hay que neutralizar pero sí que es cierto que hay también una labor pública

en relación con la coordinación y el apoyo a toda esta actividad

como se reconocía un nuevo modelo de negocios nuevos modelos de editoriales de

de comercializaciones que necesitan apoyo muchos a través de elementos convencionales como son las campañas o como son las ferias

nuevos también vinculados a las nuevas tecnologías a la información

y bueno estamos viendo cómo los planes de fomento de la lectura del libro

en españa están identificando esas cuestiones

diálogo que estamos teniendo en relación con el fomento de la lectura y del libro sea necesario algún

de continuidad algún plan de la administración a largo plazo también lo decía el gremio

la cámara del libro de euskadi decía eso esas necesidades de planificación estratégica dentro del fomento de la lectura y de continuidad de los planes a largo plazo en españa hay un plan que es dos mil dieciocho dos mil veinte no sé si será dos mil dieciocho dos mil veintiuno pero la vocación tiene que ser mayor porque los planes se suelen quedar se suelen limitar tuvimos un plan también promovido por la señora

pero era interesante pero también se concreta en dos mil once y ahí se queda

importante la referencia en relación con estas cuestiones la introducción que hace

con la situación del libro se habla de muchas de estas cuestiones que debemos identificar en relación con los nuevos paradigmas las nuevas tecnologías

los cambios sociales y culturales en relación con estas cuestiones

de fomentar planes específicos y estratégicos y en ese sentido que tanto sobre la lectura sobre la edición sobre las propias librerías es necesario que

sea un hábito de los vascos y de las vascas tiene que haber un plan yo creo que

le suena esa frase de stock trece no hay décimocuarto no hay décimotercero se me ha olvidado el trece no me ha dado tiempo a decirlo no he debido de venir bien preparado

la evaluación la recogida de datos y el análisis de esa información que los ciudadanos nos ofrecen a través de diferentes encuestas en todo momento

que debe ayudarnos a establecer nuestras prioridades yo creo que hay un cuarto si tuviéramos que hacer un plan creo que ese plan

antes hemos citado tres yo creo que uno de los vértices es la escuela y el sistema formativo y el sistema educativo creo que el segundo vértice son las bibliotecas tanto las escolares como la red de bibliotecas que tenemos en este país

colocadas y a las que recurrimos todos los ciudadanos y el cuarto vértice creo que es la familia la educación por el gusto

la facilidad de la comprensión de los contenidos es también algo que depende de padres y madres y de unidades familiares donde creo que podemos colaborar con el sistema educativo para que la capacidad de comprensión que deben tener nuestros alumnos y nuestras alumnas sea mejor

en torno a esos cuatro vértices podemos tener posibilidades para mejorar eso que nos hemos puesto como propósito principal como objetivo principal que es

creo que la referencia a las bibliotecas es importante y creo que demuestra además una apuesta que las instituciones vascas

y de forma importante la comunidad autónoma vasca es una de las pocas comunidades del estado español donde el número de bibliotecas se ha mantenido ha ido

estudia la evolución de las bibliotecas y de sus usuarios es lo que está indicando y también en ese sentido creo que es la posición que la comunidad autónoma vasca tiene en esos sistemas de bibliotecas por ser la cuarta en número de usuarios inscritos en bibliotecas a pesar de todo los datos nos indican que el número de personas que acude a ellas y que recoge libros en prestamo es menor del que aparentemente podría ser por lo tanto creo que yo

con los ayuntamientos para la adquisición de obras publicadas creo que son importantes las iniciativas que tenemos con los ayuntamientos para crear fondos bibliotecarios en aquellos municipios que no disponen de una biblioteca normalmente son municipios pequeños y creo que son importantísimas las actividades que se pueden desarrollar desde esos espacios bibliotecarios que pueden convertirse en lugares

entre bibliotecarios ciudadanos y sobre todo jóvenes personas jóvenes que pueden recibir alicientes para desarrollar mejor

creo que es también importante el trabajo que podemos hacer en la red está el proyecto de eliburutegia al que creo que debemos dar un empujón de la biblioteca nacional digital vasca al que también le vamos a dar un proyecto

como consecuencia del impulso que se planteó desde el área de política lingüística del gobierno ha habido durante un año setecientos cincuenta estudiantes trabajando

se han mejorado ochocientos setenta y nueve artículos que existían en wikipedia y se han subido a la red casi quinientos nuevos artículos nuestros jóvenes los que están en los primeros años de su educación disponen gracias a esa iniciativa de materiales de consulta referencias ineludibles que antes no tenían cuando hablamos de estas cosas a veces nos perdemos en los pequeños trozos y me gustaría darle una cifra

en este sistema de la lectura y del libro estamos este año dos mil dieciocho vamos a invertir la cantidad

que da una idea del esfuerzo que de verdad se está haciendo desde todas las instituciones

a hacer como sabe usted una interpelación sabe usted que lo hemos hablado ya en esta cámara en estos momentos en la sociedad vasca existe una reivindicación fuerte en torno a la necesidad de garantizar unas condiciones de vida digna

tercera edad estamos conociendo importantes movilizaciones impulsadas por pensionistas y jubilados reclamando medidas concretas

estas cuestiones y buscan fundamentalmente y en líneas generales que los recursos de las personas pensionistas y jubiladas sean suficientes para una vida digna

coincidirá usted conmigo que responde a una necesidad real que no es una reivindicación que proceda de un invento sino que procede de una necesidad real que ha detectado la sociedad los recortes en el sistema público de pensiones las políticas sobre el mismo y también sobre el mercado laboral

han contribuido a la pérdida de poder adquisitivo de las pensiones yo soy consciente de que las competencias en materia de pensiones las que tienen que ver directamente con el sistema no están en el gobierno del que forma usted parte y menos en su departamento sí es en cambio objeto de sus competencias lo que tiene que ver con la calidad de los empleos cuestión directamente ligada con la situación actual de las pensiones públicas basadas en un sistema de reparto de la riqueza

de las cotizaciones de las y los trabajadores cotizaciones que como también saben en su departamento perfectamente son salario diferido de las y los trabajadores la precariedad en el mercado de trabajo que usted conoce también perfectamente ha disminuido los salarios y ha disminuido las contribuciones lo que junto a las rebajas en las cotizaciones a los empleadores ha reducido los recursos del sistema de pensiones actuando sobre el mercado laboral la reforma laboral del partido popular

conquistar los salarios necesarios para tener las cotizaciones que necesitamos para unas pensiones dignas usted ocupa un lugar en el departamento de trabajo

en las relaciones laborales para que los agentes sociales puedan llegar a los acuerdos necesarios para subir los salarios y por lo tanto las cotizaciones aunque también es cierto que en estos momentos lo tiene usted muy complicado para abordar esta cuestión

con confebask del que venimos hablando también en las últimas semanas y que ha roto el diálogo social pero no obstante es una cuestión

con las reivindicaciones de nuestros mayores que también piden salarios dignos para pensiones dignas para no responder solamente que esos problemas que tienen ellos no son parte de sus competencias por otro lado en este parlamento se ha planteado desde hace algunos meses

el debate sobre la posibilidad de habilitar complementos a las pensiones en euskadi por parte del gobierno vasco como medida de respuesta ante esas reivindicaciones de pensionistas y jubilados complementos cuyo objetivo a medio plazo sería garantizar los ingresos mínimos hacia los mil ochenta euros a los pensionistas y jubilados y a corto plazo conseguir que

en euskadi por debajo del umbral de la pobreza como pasa en la actualidad esta cuestión sí es competencia de este gobierno en nuestra opinión aunque no sería competencia de su departamento sino del departamento de empleo y políticas sociales

y conozco perfectamente la respuesta a nuestra pregunta la ha explicado también el señor lehendakari en los medios de comunicación y esta

el gobierno del que forma parte tanto la señora artolazabal como usted no contempla poner en marcha una medida de esta índole y apela a la renta de garantía de ingresos que completa ingresos a un número determinados de pensionistas en nuestra comunidad una medida que no evita el mantenimiento de miles de pensionistas por debajo de ese umbral de pobreza

es que es un asunto exclusivo del sistema público de pensiones y por lo tanto que no tenemos competencias de esta manera se nos remite constantemente al congreso en madrid nosotros ya hemos explicado en varias ocasiones nuestra opinión al respecto nosotros creemos por un lado que efectivamente tenemos que actuar sobre el sistema de pensiones en el congreso y a la vez defendemos establecer complementos a las pensiones en nuestra comunidad tanto en cuanto las pensiones no alcancen los niveles necesarios para una vida digna en nuestra comunidad que tienen entre otras cosas un coste de la vida más alto que otros territorios

llevamos planteando propuestas al respecto desde izquierda unida desde hace muchos años y recientemente desde nuestra coalición unidos podemos hemos presentado diferentes iniciativas

con un veto que ha tenido el revés del tribunal constitucional que le ha dicho al gobierno de mariano rajoy que no era legal

y por otro lado recientemente sus socios de gobierno en euskadi han llegado a un acuerdo con el partido popular para posibilitar que mariano rajoy apruebe precisamente los presupuestos generales del estado un acuerdo que tiene consecuencias y

de acuerdo ya que va a permitir al partido popular seguir haciendo sus políticas en todos los ámbitos y desde luego en el ámbito laboral además no va a permitir

la entrada en vigor del factor de sostenibilidad se pospone pero no se deroga

es una acuerdo que ignora las causas de los problemas de sistema público de pensiones como son la precariedad laboral o las bajas cotizaciones a la seguridad social entre otros y que ha buscado además desmovilizar la presión de la calle una presión que va a ser un elemento fundamental para que tarde o temprano se cambien las políticas sobre pensiones

se nos dice que debemos descartar los complementos a las pensiones en euskadi como medida para evitar que todas esas personas pensionistas sigan por debajo del umbral de la pobreza y sabemos que los presupuestos generales del estado con el acuerdo entre el partido nacionalista vasco y el partido popular en madrid van a seguir manteniendo a todas esas personas en euskadi por debajo del umbral de la pobreza y desde luego muy lejos

en la calle por eso a nosotros hoy nos interesaba conocer su opinión como consejera socialista

porque nos dicen que es un asunto del congreso y su opinión sobre los acuerdos que permiten la continuidad de las políticas del partido popular que afectan y mucho a las cuestiones de las que usted tiene que encargarse al frente de su departamento de trabajo

sigan en esas condiciones muchas gracias eskerrik asko hernández jauna

señor hernández antes de responder a su interpelación le haré algunas consideraciones que me parece oportuno señalar el decreto

y de determinación de funciones y áreas de actuación de los mismos es el que regula las competencias departamentales

seguridad social en los términos previstos en el estatuto de autonomía

legislatura se encuentran la reclamación y negociación

en los términos de la disposición transitoria quinta del estatuto

competencias y desde la preocupación por el futuro de las pensiones públicas preocupación que nos ocupa a todos y a todas le voy a responder

sobre la situación de los y las pensionistas y sobre la conveniencia o no de complementar las pensiones hasta un mínimo de mil ochenta euros voy a comenzar

la idea de sistema de pensiones que defiendo y luego le hablaré sobre la cuantía mínima de la pensión yo defiendo el sistema público de pensiones

otra cosa son los problemas con los que se encuentra que luego comentaré también defiendo el sistema público de pensiones porque es el único que garantiza que todas las personas independientemente de su condición social puedan tener acceso a una pensión digna por otra parte es un derecho recogido en la constitución

este sistema es viable y sostenible si se basa en la solidaridad intergeneracional y territorial si se dota de las aportaciones necesarias y si las políticas económicas de empleo y de condiciones laborales acompañan adecuadamente en años muy recientes

ha producido importantes excedentes que han constituido

de carácter social y solidario un sistema

trabajadores y empresas lo hacen para que cobren su pensión los actuales pensionistas y ellos la cobrarán con lo que coticen otros

que por cierto debería activarse y fortalecerse porque el pacto de toledo es el lugar natural donde debe abordarse la cuantía de la pensión mínima

la que ya existen referencias con más o menos consenso y habría que concretar cuantía periodo de consecución y garantías de financiación

si queremos unas pensiones públicas para todos suficientes y solidarias es un error pretender localizar parcialmente su solución seguro que coincidimos en que en esta sociedad hay sectores políticos

hacia otros sistemas alternativos basados en las aportaciones a planes privados de capitalización planes privados que dejan fuera a los más desfavorecidos a los que no pueden ni aportar ni generar el ahorro suficiente para vivir dignamente al acabar su vida laboral

le decía antes señor hernández que sistema que yo defiendo está acusando problemas que lo ponen en cuestión

la devaluación de los salarios o el debilitamiento de la negociación colectiva son algunas de las causas que producen que los costes de mantenimiento del sistema público de pensiones

para superar esta situación es preciso aplicar medidas que tengan una fuerte carga de voluntad política que se aborde globalmente que se trate como lo que es un problema de país y esto nos lleva y llevará otra vez al pacto de toledo porque estamos hablando de uno de los pilares

y su viabilidad se basa en la redistribución de la riqueza generada en el país me preocupan y mucho los y las pensionistas

un proceso de empobrecimiento que tienen ingresos por debajo de lo que se considera el umbral de la pobreza a los que el estado no responde con los incrementos

de actuar pero también creo que la solución definitiva va a venir entre otras cosas porque se cree empleo de más calidad reduciendo los empleos temporales y los de tiempo parcial en definitiva que los jóvenes

con mejores salarios y más estables que se impulse la negociación colectiva para que se incrementen los salarios de los y las trabajadoras que exista una verdadera concertación y un diálogo social que

en valor el pacto de toledo también creo que las pensiones no contributivas determinados gastos de gestión y políticas de subvención a la contratación pueden y deben financiarse desde los presupuestos generales del estado paralelamente hay que afrontar las situaciones de pobreza a las que me he referido antes

encuentro dos días para superar esas situaciones por una parte mantener el compromiso con el sistema público de pensiones y por otra parte para reforzarlo nuestro sistema de protección social este segundo es un debate que está pendiente de suscitarse en esta cámara y sobre el que ustedes tienen la última palabra

mantener y fortalecer el sistema público de pensiones que las pensiones alcancen los ingresos suficientes para garantizar una vida digna

necesarios los subsidios los responsables de la situación que viven muchos de las y los pensionistas son los que aplicaron en medicamentazo los que han recortado las ayudas

y los que anunciaron una subida del cero coma cinco por ciento de las pensiones otra de las cuestiones que se suscitan a la hora de afrontar estos debates

recomendaciones de la carta social europea estas recomendaciones deben constituir un referente de actuación

las herramientas de las que nos dota el autogobierno para alcanzar el objetivo relacionar las pensiones con el salario mínimo interprofesional incrementarlas en función del índice de precios al consumo y como le decía completarla con los instrumentos propios de nuestra autonomía

la vida digna de los y las pensionistas no voy a entrar en más detalles como le decía al principio de mi intervención no quiero abordar temas que no son de mi única competencia

una proposición de ley que han presentado los grupos que apoyan al gobierno y que contiene una renta de garantía diferenciada para los y las pensionistas una renta de garantía
que aumentará el complemento de ingresos que estoy convencida va a suponer una mejora sustancial eskerrik asko

sí señora san josé yo creo que más o menos ya conocía

público de pensiones que además en una buena parte al menos de lo que ha dicho usted aquí yo comparto pero mi interpelación no era en ese sentido yo

le interpelaba por dos cuestiones una era si usted está de acuerdo con la decisión de su gobierno de que el complemento a las pensiones

no es una herramienta válida para garantizar en nuestra comunidad que las y los pensionistas lleguen a ese nivel de ingresos que consideramos

ingresos dignos y suficientes después de que usted misma ha dicho que garantizar

y que está en la constitución por lo tanto entendemos que solo a través del sistema público de pensiones actual debemos garantizarlo y yo estoy de acuerdo si esto es posible

cuestión nosotros pensamos y no sé si usted coincide y por eso se lo preguntamos

precisamente va a desactivar que se pueda avanzar a corto plazo en ese sentido porque usted apela al pacto de toledo y nosotros pensamos que es muy posible en los últimos años el pacto de toledo ha sido totalmente ninguneado por el partido popular que ha hecho reformas saltándose el pacto de toledo nosotros pensamos que tal vez una vez

esa reivindicación concreta de actualizar las pensiones con arreglo al ipc para estos dos años ahí va a tener el gobierno en madrid el argumento perfecto para no activar el pacto de toledo y hacer las reformas que le venimos reclamando desde la izquierda

que la opinión de los dos socios del gobierno sobre esta cuestión no es la misma y creo que esta cuestión no forma parte del acuerdo de gobierno que tienen ustedes y por lo tanto entiendo que no le estoy pidiendo a usted

si nos da su opinión como consejera de trabajo sobre esa cuestión que nos va a afectar sobre todo teniendo en cuenta que como usted misma ha dicho

será una cuestión de la que se tendrá que encargar usted si sigue al frente de ese departamento

señor hernández yo también conocía cuál era su posición con respecto a este asunto entonces bueno sí que reiterar

sigo insistiendo en que me siento desde luego identificada con muchas de las reivindicaciones de los y las pensionistas que en los últimos meses se viene movilizando

para quienes están cobrando pensiones que no les permiten llevar una vida con la dignidad suficiente que la situación que se ocasiona

la mitad de los ingresos es denigrante insisto en lo que he dicho en mi primera intervención

cual es la herramienta válida insisto en que lo importante es que el sistema público de pensiones funcione y ofrezca

que se avance hasta lograr implementar las recomendaciones de la carta social europea que la pensión

estén relacionados para asegurar que no hay una pérdida real de ingresos

lo importante es que los y las jóvenes puedan plantearse un horizonte de vida estable y de calidad

que se revitalice la negociación colectiva la concertación y el diálogo social como garantes de una mejora de las condiciones de vida con los trabajadores y trabajadoras

habrá que arbitrar otras medidas en el caso de nuestra comunidad ponemos al servicio de estos objetivos los instrumentos que tenemos y otros

los recursos son escasos y a falta de que el estado provea de los medios para abordar la situación en su totalidad tenemos la obligación de responder se ha articulado

por el repago farmacéutico existen ayudas que garantizan el derecho a la vivienda y tenemos prestaciones complementarias o ayudas de emergencia social todo ello con la reforma que se plantea de la renta de garantía de ingresos hará que se pueda equiparar pensión mínima con salario mínimo interprofesional y superarlo en el caso de las beneficiarias sean dos quiero partir

tanto usted como yo defendemos el sistema público de pensiones unas pensiones dignas

movilizaciones en otras comunidades autónomas como la de navarra se ha aprobado una ley que ustedes apoyan y que garantiza unos ingresos mínimos de setecientos cinco euros

pero no seré yo quien cuestione su compromiso con las y los pensionistas

es a que reflexione sobre por qué no ponen en práctica donde gobiernan lo que aquí predican por mi parte seguiré defendiendo lo que he manifestado

y desde luego aplicando las competencias asignadas al departamento de trabajo y justicia que me corresponden eskerrik asko eskerrik asko

concernidas y a todas las partes implicadas la máxima responsabilidad y colaboración para buscar la mejor solución a la situación que padece en estos momentos la naval de sestao a corto plazo la supervivencia del astillero pasa por asegurar la construcción de la draga buque trescientos cuarenta y siete lo que conlleva la necesidad de un acuerdo rápido y efectivo

a las condiciones técnicas económicas y temporales previstas inicialmente